lo que ha ocurrido estas últimas cuarenta y ocho horas no sé cómo calificarlo porque el labi técnico dice que no hay que tomar más medidas que no hace falta reunir al labi político

y nos dice que no descarta tomar medidas más restrictivas y se filtran a la prensa las posibles medidas que

en la reunión de hoy no parece muy serio señor urkullu

si no tenemos la capacidad suficiente para proteger a la gente algo habrá que pensar

la voluntad libre y democráticamente expresada de la ciudadanía y el anclaje de los derechos históricos

y un blindaje efectivo de nuestras decisiones

sino el derecho a decidir de este pueblo todo lo demás serán parches son parches ya lo ve sin ninguna garantía para poder proteger a la gente como tenemos que hacer

es cierto que el estado de alarma condiciona nuestra capacidad y ante ello estamos proponiendo

que aporte seguridad jurídica y eficacia a las decisiones que adoptemos para frenar y superar la pandemia este es nuestro nuevo instrumento al que espero que todas y todos puedan porque es necesario un escenario de colaboración eskerrik asko

en esta época al gobierno se le ocurre la idea de poner la alfombra roja a una universidad privada en plena pandemia

que nunca cuando la desigualdad se agrava y el sistema se colapsa la excelencia para ustedes es privatizar más momentu honetan behar duguna

de salud y educación potentes para una sociedad más justa porque a qué necesidad educativa real responde a la creación de la euneiz la pregunta se responde sola

unibertsitatea da la necesidad responde al único interés de ánimo de lucro de una sociedad anónima unipersonal que es la promotora de este proyecto una entidad que detrás de ella está el señor josean kerejeta la inmensa mayoría de la oferta

en euskadi muchas de ellas en la propia ciudad de gasteiz lo que el gobierno vasco nos trae al parlamento es un proyecto de reconocimiento de una pretendida

privada diseñada a capricho porque si esto falla quién va a asumir las consecuencias la ley del sistema universitario vasco reconoce tres universidades una pública y dos privadas privadas sí pero sin ánimo de lucro cosa bastante diferente a este proyecto

pero con arraigo con trayectoria con conexión con el tejido socioeconómico vasco no es el caso de este proyecto va a realizar entonces cambios el gobierno en la ley del sistema universitario vasco este informe

la agencia evaluadora de la calidad del sistema universitario vasco creo que es bastante de fiar este informe es desfavorable a la tramitación de la memoria del proyecto de la universidad unibasq ek unibertsitateei buruzko irizpidea emateko legez aztertu behar dituen

ez ditu betetzen kapritxozko uneiz unibertsitateak no tiene una oferta mínima de titulaciones ni una programación

no son los adecuados y una de las conclusiones de este informe es que esto no es una universidad sino que como mucho será un centro podrá ser un centro adscrito a una universidad

que no analiza la memoria de esta universidad sino que analiza su proyecto de ley que bueno pues cumple la legislación pero esta memoria no lo cumple

las condiciones para reconocer lo que es una universidad y lo que no es una universidad por tanto si con las actuales condiciones que son bastante laxas

nuestro grupo parlamentario no cumple lo que son los requisitos para ser una universidad

universidad constituida como centro adscrito porque en estas condiciones

esto no es una universidad eskerrik asko martínez zatón jauna

señor martínez lo que es muy importante a la hora de hacer parlamentarismo es el rigor dentro del expediente que usted

en estos momentos se han podido adoptar todas las medidas correctoras pertinentes y gracias

el preceptivo informe de la conferencia general de política universitaria es afirmativo el informe de unibasq al proyecto de ley

no solo eso el paraguas jurídico que regula la creación de universidades privadas está establecido en el artículo veintisiete de la constitución en su punto sexto apartado sexto

dentro del respeto a los principios constitucionales así también el artículo quinto de la ley orgánica de universidades

de creación de reconocimiento autorización y acreditación de universidades y centros universitarios

considero positivo que debatamos con argumentos sobre este proyecto y sobre esta idea cómo mejorar la educación y cómo mejorar la universidad vasca considero positivo que debatamos sobre el sistema universitario vasco y su futuro un modelo la universidad pública y la universidad privada un modelo que se ha demostrado eficaz y ha situado a la universidad vasca entre las instituciones mejor valoradas de nuestro país

sobre cien según el sociómetro vasco de dos mil diecinueve estoy seguro de que en este debate vamos a poder compartir el mismo argumento de una gran autoridad en esta materia

y cito textualmente señor martínez estoy a favor de las universidades privadas si son de calidad y esto lo decía que yo comparto este mismo criterio

en el país este es el mismo reto y es el mismo argumento de nuestro gobierno mejorar la calidad de la educación la universidad

en su conjunto me gustaría también poner de manifiesto aunque seguro que lo conocerá

existe un apartado también que posibilita y da más opciones también a las universidades privadas para su creación sobre la premisa de la garantía de la calidad

estoy seguro de que vamos a ser capaces de seguir mejorando juntos el modelo universitario vasco eskerrik asko eskerrik asko bildarratz jauna

presidenta señorías señor consejero de comercio turismo y consumo hoy hablamos de la mascarilla

dijo que nadie puede llevar una máscara durante mucho tiempo

en primer lugar hace mucho tiempo que la llevamos y porque además yo por lo menos tengo la impresión de que ha venido para quedarse y que con otros usos

importante para preservar la salud estamos hablando además de un producto que probablemente es muy singular porque quizás en tiempo real nunca toda la ciudadanía

y por eso en el departamento que usted gobierna a través del instituto vasco de defensa del usuario y el consumidor kontsumobide el reto la labor

por estas cosas que estoy diciendo la mascarilla de alguna forma ha sido impuesta desde el punto de vista político sanitario

la mascarilla tiene un coste económico que grava

no se puede utilizar a capricho sino que

o su uso incorrecto además la ciudadanía ha tenido que salvar la incomodidad de tener que vivir de esta manera que nunca

hecho y por lo tanto digamos que estamos ante un deber de carácter cívico de carácter sanitario de carácter solidario

que la ciudadanía tiene en este tiempo y parece razonable a un deber acompañarle con un derecho que es el derecho a saber qué está protegido y a saber que protege a los demás en estos momentos hay muchas dudas sobre los niveles de protección de muchas mascarillas que circulan por ahí hay incluso quien ha pensado que esto simplemente se trataba de un negocio y por lo tanto aquellos que fabrican y aquellos que comercializan tienen que hacerlo con todo el rigor porque estamos hablando de salud y estamos hablando de vida que además es una de las primeras obligaciones de cualquier gobernante garantizar el derecho a la salud el derecho a la vida

los modelos los tipos los materiales con los que se confeccionan

a veces se llama homologación a cualquier cosa es absolutamente imprescindible que

medidas y que junto a las dos campañas que ya ha realizado su departamento y que ha generado preocupantes resultados

dé una vuelta de tuerca precisamente porque hay una nueva normativa

de consumo que entra en vigor el día treinta de este mes y que eso permite ir todavía mucho más allá y por eso en este parlamento lo que queremos es

de esa vida y en defensa también del derecho del consumidor a saber qué está protegido y que protege en qué va a consistir esta tercera campaña muchas gracias

efectivamente llevamos ya un año viviendo en un escenario de pandemia que ha servido entre otras cosas de aprendizaje sobre el comportamiento del virus y la efectividad de las medidas sanitarias

aún ahora tenemos que seguir aprendiendo porque surgen nuevas cepas vacunas estudios que nos llevan a tener que convivir con la incertidumbre la flexibilidad y el aprendizaje continuo

en la contención del virus al principio su uso fue controvertido pero hemos ido aprendiendo y también la industria y la normativa han tenido que ir adaptándose y especializando

y las autoridades competentes en control e inspección del mercado debemos estar especialmente vigilantes y de nuevo hay que ser honestos no siempre es sencillo porque entran en juego diferentes administraciones competencias y legislación que a veces

dentro de nuestras competencias vigilar un producto que iba adquiriendo cada vez mayor protagonismo

desde el punto de vista de medidas sanitarias y también de evolución del mercado y de producto de mascarillas estas campañas analizaron la situación del etiquetado en la comercialización de las mascarillas higiénicas y epi

detectamos muchos incumplimientos en el etiquetado que fueron subsanados pero consideramos

una nueva campaña con carácter sancionador esta campaña se basa en la ya nueva orden sobre etiquetado y características de las mascarillas higiénicas del ministerio de consumo que entra en vigor el día veintinueve por tanto

la nueva campaña inspectora el treinta es decir el martes de la próxima semana además ante la alarma creada con la comercialización de las conocidas como mascarillas de rejilla

y preventivamente ya realizamos un análisis de laboratorio de una marca y comprobamos que la filtración bacteriana que marcaba su etiquetado del noventa por ciento era en realidad del quince por lo que las retiramos del mercado y decidimos considerar esas mascarillas como objeto prioritario de inspección por tanto

el día treinta se va a caracterizar por varios puntos en primer lugar vamos a hacer especial hincapié

segundo va a ir más allá del control del etiquetado y va a contemplar la toma de muestras para su envío al

tercero va a ser una campaña sancionadora ya que el mercado y la normativa han tenido

y cuarto queremos que sea una campaña rápida por lo que hemos establecido un procedimiento ágil

para que los procesos lleguen a buen puerto debemos mantener todos los plazos administrativos para alegaciones plazos de análisis de laboratorio y los de protocolo de comunicación y red de alertas por ello

como digo cumpliendo siempre todos los procedimientos y no me alargo más pero quiero recordar que nos encontramos ante una situación

debemos extremar el cuidado de la salud de las personas y la preservación de sus derechos a una información

y en lo que atañe a mi departamento estamos trabajando para reforzar esta labor de vigilancia

para garantizar efectivamente que ninguno de estos derechos sea vulnerado eskerrik asko eskerrik asko hurtado jauna

el tema de los fondos europeos los días previos existía cierta tensión a cuenta de la gestión de esos fondos lo recordará pero al acabar parecía abrirse

soleado de socios bien avenidos días después aquí en el debate de presupuestos

molestos controles parlamentarios con eso y un crecimiento prometedor desdeñaron nuestras ochocientos cuarenta enmiendas que presentamos desde la coalición partido popular ciudadanos

y en tanto gasto nacionalista para atender a los sectores más golpeados por la pandemia lo suyo era apalear millónes y listados unilaterales de proyectos a financiar con fondos europeos han pasado solo dos meses lehendakari dos y aquellas soleadas horas de moncloa

de los fondos europeos sabemos más o menos lo mismo es decir no hay avances hay malestar en las comunidades autónomas pero es que a nosotros nos contaron y usted nos contó

y ahora incluso el señor azpiazu critica el diseño unilateral impositivo para el reparto de los fondos europeos

se aplique bien y a quien se lo merece vamos que no se fían de sus socios pero es que el señor sánchez es su socio lehendakari está donde ustedes el partido nacionalista vasco le pusieron y quisieron que estuviera todos sabemos que en los fondos europeos hay mucho en juego y el gobierno

y los vascos somos los paganos tan perjudicados como el resto de los españoles de la actuación de un socio tan poco fiable a pesar de su relación privilegiada por eso

en relación con la llegada y gestión de los fondos europeos y si me lo permite visto lo visto qué alternativas maneja pensando en nuestros presupuestos eskerrik asko iturgaiz jauna

que para la preparación y aplicación de los planes estatales se debe hacer partícipes a las autoridades regionales y locales y consultarlas debidamente

no ha procedido a realizar con profundidad esta consulta a las comunidades en esta fase españa será uno de los primeros países de la unión europea en presentar su plan ha preferido llegar el primero tal y como se nos dijo en la conferencia de presidentes celebrada en san millán de la cogolla el treinta y uno de julio del año pasado

en una comisión en la que participaran las comunidades autónomas nuestra valoración es que hubiese sido mejor ir acompañado por las comunidades para llegar más lejos las comunidades contamos con estrategias de especialización inteligente promovidas por la propia comisión europea

contamos además con competencias exclusivas en materia de políticas públicas

por lo que nuestra participación en el diseño de las líneas de inversión que les afectan es indispensable tenemos tiempo

esto permite poner las luces largas para intensificar el uso de los fondos para la transformación y la resiliencia más allá de la recuperación

pero igual tienen que colocar las luces de niebla porque yo creo que hay un oscurantismo en estos momentos lo que está ocurriendo con sus socios de gobierno

europeos porque yo creo que hay motivos de y para la preocupación ustedes están poniendo creo que el parche antes que la herida se lo digo ayer mismo

declaraba que hay un riesgo que con los fondos europeos suceda lo que está ocurriendo con las vacunas fíjese qué mensaje está lanzando pero es que usted ha citado aquí en esta tribuna

y para colmo el delegado del gobierno el señor itxaso le dice

y que ustedes o que quieren confundir a la sociedad con ese tema

sus socios sus socios entonces ante esta situación yo creo que siempre que nos pide que rememos conjuntamente yo le hago una propuesta por eso yo le invito a sacar la única conclusión posible ante el retraso de los fondos europeos primero

y pongámoslos al servicio de los sectores más golpeados y más dañados por la pandemia y segundo exija con nosotros lehendakari al señor sánchez

se cree una autoridad independiente para gestionar las ayudas

para así acabar con el oscurantismo y las mentiras de sus socios de gobierno

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor iturgaiz nosotros no tenemos unos fondos next nosotros tenemos unos presupuestos generales aprobados

tenemos un fondo covid tenemos un proyecto

en todo caso señor iturgaiz yo creo que nos encontramos en una carrera de fondo que no ha hecho más que empezar y lo miro con un espíritu positivo entendemos beneficioso que el gobierno español comunidades autónomas entidades locales juguemos un papel más activo en el diseño distribución y ejecución de los fondos como lo estamos reivindicando

la estrategia práctica más eficaz en el marco de unas políticas públicas a las que usted ha hecho referencia que nos corresponde codecidir con el estado con el gobierno español euskadi está y va a seguir estando dispuesta a aportar en la definición de un plan que siente las bases para el progreso y la prosperidad de las generaciones futuras esta es

la misión que compartimos plenamente de hecho

estamos realizando un profundo trabajo de planificación e identificación de ámbitos estratégicos así ha sido reconocido por el propio gobierno español

necesitamos certidumbre para planificar y comenzar a desarrollar los proyectos que permitan optimizar los fondos europeos no podemos permanecer estáticos
insisto que estamos a tiempo y vamos a seguir empeñados en conseguirlo y poner en marcha las iniciativas a la mayor brevedad eskerrik asko eskerrik asko

gracias presidenta señor lehendakari consejeros parlamentarios

un modelo que potencie la reinserción y el cumplimiento de las penas en semilibertad hitzeman la vía legal es un programa de apoyo a los procesos legales de resocialización de personas presas por terrorismo

los beneficios de este programa orientado en exclusiva a los presos que han formado parte de la banda terrorista eta se comparten con el resto de presos ordinarios eskerrik asko

que sirvió de base a una experiencia piloto en materia de reinserción y de resocialización de personas presas

desde marzo de dos mil quince se desarrolló durante más de dos años

no está en vigor pero sus conclusiones serán tenidas en cuenta a la hora de definir el modelo penitenciario en euskadi esta experiencia piloto se desarrolló en dos ámbitos

de reintegración social desde la perspectiva asistencial estuvo dirigido

con independencia del delito que hubieran cometido y reinserción

porque como usted sabe la legislación establece requisitos diferenciados para estos supuestos eskerrik asko lehendakari jauna eskerrik asko

si no hubiera existido la banda terrorista eta y usted lo sabe precisamente ahora además que ha dejado de matar ahora que los presos no son un quebradero de cabeza para el gobierno y que además puede apuntarse el tanto esto señor urkullu es puro oportunismo político el programa hitzeman

el subtítulo mostraba de una forma clara la orientación o la tendencia del documento la vía legal le llamaban como si la política penitenciaria del gobierno de españa con los terroristas de eta hubiera sido ilegal posiciona al gobierno vasco como muñidor de una fantástica esa solución que pasa inexorablemente por que los terroristas en prisión salgan a la calle

solo confirmar un documento tipo corroborando una especie de acto de fe colectivo ya que todos firman el mismo adquirirán beneficios penitenciarios de primer orden

la única manera de mostrar el arrepentimiento tendría que ser la de contribuir con la justicia en el esclarecimiento de los trescientos setenta y nueve crímenes sin resolver decir

quiénes colocaron las bombas decir dónde y qué hicieron con las personas desaparecidas para que más pronto que tarde paguen por los delitos cometidos

cuyos predecesores fueron una parte activa de la generación del terror vamos a decirlo claro haber matado en nombre de eta le garantiza una política de reinserción de primera categoría con prestación complementaria de vivienda y rgi

es un miembro numerario más de los asuntos sociales

aquí el gobierno vasco se prepara para que una vez estén en el tercer grado sean internados en alguna de las tres cárceles del país vasco y una vez así conseguirles vivienda y facilitarles la vida con la rgi para qué van a trabajar señor urkullu

ninguna de las cincuenta y nueve resoluciones aprobadas en la sesión plenaria del pasado trece de marzo del dos mil diecinueve hablaban sobre el modelo penitenciario que nosotros necesitábamos pero no hacían alusión a los miembros de eta

sí pone el acento en ellos no ofrezca una carta de legitimación a los terroristas señor lehendakari la sociedad vasca no nos lo merecemos

pero hágalo para contribuir al esclarecimiento de los trescientos setenta y nueve crímenes cometidos aún sin resolver para erradicar los homenajes a terroristas y por supuesto para hacer un relato de la historia veraz

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez luego le haré la referencia
al porqué de la insistencia en la transferencia

cuarenta y uno años en todo caso señora martínez a usted cabría aplicarle el dicho de que que la realidad no le estropee un titular en algún medio de comunicación mire yo entregué personalmente

que estuvo en vigor el programa hitzeman durante dos años por lo tanto en un gobierno

la secretaría general de instituciones penitenciarias y el juzgado central de vigilancia penitenciaria conocieron desde el primer momento el planteamiento desarrollo y seguimiento del programa hitzeman un programa que se situó en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y de la corriente europea de la justicia restaurativa y es que ese es nuestro modelo

está documentada y publicada es accesible y es transparente

el índice de la publicación es muy ilustrativo proyecto clarificación del pasado víctimas memoria política penitenciaria educación

contribución internacional y como anexo desarme y disolución de eta le recomiendo su lectura en este caso del libro quinto de este que le estoy enseñando que recoge toda la actuación desarrollada en política penitenciaria y más en concreto

usted sabe señora martínez que la constitución española en su artículo veinticinco punto dos establece que la función de la pena debe ser la reeducación

usted sabe que la ley orgánica general penitenciaria señala que la política penitenciaria debe basarse en los principios de individuación humanidad y reinserción

ley orgánica prevé la transferencia de la competencia de centros penitenciarios al gobierno vasco en cumplimiento de lo que establecen sus artículos diez punto catorce y doce punto uno el programa hitzeman se basó en este marco normativo el modelo penitenciario de euskadi también seguirá teniendo en cuenta este marco un marco que se lo recuerdo ha de estar basado en los principios de individuación humanidad

un marco enfocado a la resocialización y la justicia restaurativa eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

lehendakari jauna los hechos acaecidos tras las elecciones

precipitando el cambio de régimen en españa y la proclamación de la segundo república son de sobra conocidos

también el papel relevante que jugó una ciudad vasca en aquellos días me refiero como se puede imaginar a la ciudad de éibar

hace noventa años la localidad vasca de éibar asistió de madrugada en la actual plaza unzaga

éibar se convirtió en el primer ayuntamiento que proclamó la

el nuevo consistorio se reunió y tomó las primeras y simbólicas decisiones entre ellas el cambio del nombre de esa misma plaza que hasta entonces se llamaba plaza alfonso trece

de la república desde ese instante los cambios se sucedieron vertiginosamente en todo el país vasco en todo el estado y a las cinco de la tarde ya se había proclamado la

a eso de las seis de la tarde se confirmó la proclamación oficial de la

por lo que una vez confirmada desde donostia la noticia de la proclamación oficial de la república se decidieron a habilitar una gran escalera y colocar

del ayuntamiento para la nueva plaza de la república mientras la población acompañaba a la banda municipal coreando

la internacional y el gernikako arbola éibar se mantuvo en la vanguardia en la apuesta por vientos nuevos

el dieciocho de abril de mil novecientos treinta y uno cuando en muchos lugares

el ayuntamiento de esta ciudad guipuzcoana lanzó su primer bando en el que se pedía la reforma del código político para solicitar el estatuto en otra localidad vasca

acudía junto a cientos de vecinas y vecinos al puente internacional sobre el río bidasoa a recibir a una multitud de vascas y vascos exiliados del otro lado de la muga así la ciudadanía dio comienzo al derribo de un régimen monárquico corrupto que hacia aguas en lo social y en lo político el pueblo exigía mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y decidir su destino un cambio de modelo de estado que no se quedó

históricos fruto de la decadencia monárquica

la lista de avances es larga y entre esos avances el reconocimiento de la autonomía política vasca por eso el noventa aniversario de la proclamación de la

estamos ante unos hechos históricos y políticos de trascendencia fundamental para el devenir de euskadi

del gobierno vasco la constitución de mil novecientos treinta y uno que nació de los principios y valores republicanos

protección a la maternidad y a la infancia o la garantía a las trabajadoras y trabajadores de una existencia digna mediante protección en casos de enfermedad accidente paro forzoso vejez invalidez o muerte dio acceso a una educación pública gratuita y universal a toda la ciudadanía

también al aborto y se legalizó el divorcio la

nacía por lo tanto con la vocación de transformar radicalmente la realidad y construir una sociedad moderna identificada con la democracia

con los derechos humanos y con la justicia social la república nacía con la vocación de transformar radicalmente la realidad de un país casi feudal haciendo efectivo el tránsito de siervos a ciudadanos con derechos

y la voluntad popular se acreditó también con la elección popular

de la república el único jefe de estado elegido democráticamente en la historia del estado

constitucional el diez de mayo de mil novecientos treinta y seis se materializaba por primera vez por lo tanto

la constitución de la república recogió los principios del parlamentarismo de la europa de entre guerras la preminencia del poder legislativo expresión de la voluntad general

ejecutivo o gobierno el parlamento se convertía por primera vez en el centro de la vida política e instancia de control a un gobierno la república extendió la democracia constitucionalizando el referéndum legislativo para que las personas pudieran decidir sobre las leyes votadas en el parlamento

de derechos también en ámbitos privados como el matrimonio la educación la familia el trabajo o la economía

el matrimonio civil con igualdad de derechos y deberes de los cónyuges o el divorcio la constitución republicana supuso el acceso de todo nuestro pueblo a la cultura

de todas las personas para conseguirlo se estableció el carácter obligatorio de la educación básica pública gratuita y laica lo que significó

en la historia del estado español y la segunda república supuso también el inicio de un modelo de estado

del poder y la llegada en ese ámbito del autogobierno vasco con todas sus vicisitudes con todas sus luchas políticas con todas sus contradicciones

del primer estatuto y del primer gobierno vasco encabezado

por el lehendakari aguirre miembro de su partido y en cuyo gobierno participaba también con la cartera

ojalá que nuestro país siga avanzando en un horizonte republicano de plena garantía de los derechos esenciales no solo los civiles y políticos que deben desarrollarse hasta acabar con cualquier tipo

para que todas las personas sean iguales ante la ley y también para que todas las personas puedan acceder en igualdad de condiciones a las más altas instituciones del estado ojalá sea también una realidad avanzar

de un estado que materialmente es plurinacional y también para que alcancemos la garantía plena de los contenidos de los derechos económicos imprescindibles para que todas las personas tengan una vida plena y digna pero para ello es necesario reconocer el valor de lo que fue un punto de inflexión en la historia democrática de nuestro país el noventa aniversario de la proclamación de la

no es una efeméride cualquiera no es una efeméride más es el aniversario de un hito de trascendental relevancia para el devenir histórico de nuestro país si queremos mirar

pensamos que debemos mirar a la historia democrática de nuestro país y ahí la proclamación de la segunda república tiene un papel

qué valor concede el gobierno vasco al noventa aniversario una fecha redonda de la proclamación de la

nazio aniztasun errealitateari buruzko edozein hausnarketa politiko el golpe de estado se rebeló ante la legalidad de la república de mil novecientos treinta y uno

mutiló de raíz los avances sociales que se habían logrado con anterioridad

a su vez cualquier reflexión política abierta respecto a la realidad plurinacional del estado español al que usted ha hecho referencia también un estado en el que cohabitaban y siguen cohabitando hoy en día naciones distintas como la vasca o la catalana la consecuencia del golpe fue una sangrienta guerra civil en la que los golpistas

en este caso además la legión cóndor bombardeó diferentes municipios vascos el próximo día treinta y uno de marzo recordaremos el bombardeo de durango

los más conocidos internacionalmente aunque hubo más de una treintena desde el primero que tuvo lugar en otxandio y que es justo reconocer

que sufrieron también los efectos de un bombardeo indiscriminado o discriminado en definitiva guerra sangre y desolación y además la dictadura franquista y la oscuridad de su negro túnel autoritario que duró

aprovecho esta ocasión señor hernández para manifestar en este foro parlamentario ante todas y todos ustedes quienes nos estén escuchando un respetuoso agradecimiento

las mejoras y los avances para la sociedad en general todos ellos fueron sepultados de forma

aprovecho también la ocasión para remarcar que en aquellos momentos hace noventa años

contaban con una gran implantación social ambos partidos esto es la actual composición del gobierno vasco apoyaron con firmeza la legalidad democrática

el lehendakari aguirre al que usted ha hecho mención conformó un primer gobierno vasco plural y abierto con la participación de los partidos que defendían la legitimidad de la república

y el autogobierno vasco partido nacionalista vasco partido socialista junto con el partido comunista anv y los partidos republicanos se opusieron frontalmente a los golpistas muchos gudaris y milicianos

este aniversario nos ofrece también la oportunidad de dedicarles nuestro recuerdo

los partidos que sustentan el actual gobierno vasco por lo tanto junto al resto de partidos que lo conformaron resistieron a la dictadura durante cuarenta largos años en la dura clandestinidad

y nos legaron el testigo de la democracia la esperanza los avances sociales la libertad y el autogobierno de euskadi

y a partir de la conformación del nuevo gobierno vasco el objetivo resultaba claro apostar por la esperanza la recuperación de la libertad la restitución de la democracia y del autogobierno de euskadi

hemos tratado de dar continuidad a este camino lo hemos hecho con aciertos y errores sin duda

que recibimos nuestro empeño sigue siendo legar un futuro mejor a nuestro pueblo honestamente este es el mejor homenaje que podemos tributar noventa años después

los valores republicanos que usted cita son nuestros valores no puedo más que coincidir con ellos han estado siempre presentes en el ideario del gobierno vasco también

así garantizar los derechos sociales proteger a quienes más lo necesitan o favorecer una existencia digna para todas las personas

y forma parte de nuestro programa desde hace cuarenta años desde los mismos albores de la transición política el gobierno vasco quienes alternativamente han y hemos participado de este ejecutivo hemos apostado todas y todos irrenunciablemente y en la medida de nuestras posibilidades

y es así señor hernández que de hecho considero que mantener este ideario es el mejor homenaje y reconocimiento que podemos hacer al espíritu de la república eskerrik asko

eskerrik asko lehendakari jauna nos parece que más allá de

los valores que yo no voy a criticar que luego

discutir sobre la visión que cada uno tenemos sobre cómo se llevan a la práctica ese tipo de valores pero nosotros pensamos que la segunda república como le decía antes y el noventa aniversario una fecha redonda de la

es una fecha de una trascendencia fundamental

de esos valores y para la historia democrática de nuestro país sobre la que los diferentes grupos de esta cámara también tendremos diferentes visiones pero creo que es una fecha de indudable trascendencia y por eso nosotros lo que pensamos

ustedes nos trasmitan que el gobierno en su ideario incluso en su programa recoge esos valores pensamos que el gobierno vasco tiene que jugar un papel a la hora de poner en valor lo que para nuestro pueblo fue el advenimiento de la

y lo tiene que poner en valor con actos concretos con acciones concretas que tengan trascendencia y que permitan también a la sociedad conocer el papel que supuso y que supone en nuestra historia democrática

de las acciones que se hacen en relación al reconocimiento

y a lo que fue la contienda ante ese golpe fascista sabe usted además

a nuestro grupo nos suele ocupar bastante pero hoy estoy hablando de un hito histórico que es la proclamación de la

relacionados pero el papel que jugó el advenimiento de la segunda república en nuestro país

es un punto de inflexión en como le decía la historia democrática

de recordar cómo defendimos o cómo defendieron esa legalidad democrática y aquellos valores sino se trata también de reconocer cómo llegaron y lo que supusieron cuando llegaron y por eso nosotros lo que voy a aprovechar para pedirle a su gobierno es que hagan un reconocimiento en el noventa aniversario una fecha redonda de la

que el gobierno vasco y el pueblo vasco tiene que hacer aquel punto de inflexión tan importante en nuestro devenir histórico que no se está haciendo pensamos que no se ha programado es cierto sabemos conocemos la situación en la que estamos sabemos cómo condiciona la pandemia y que las prioridades son otras pero pensamos que el gobierno tenía que haber sido

a la hora de impulsar un reconocimiento explícito a lo que supuso la segunda república por eso elkarrekin podemos izquierda unida invitamos a su gobierno a que así lo haga y también le adelanto que

de alguna manera haga ese reconocimiento a lo que pensamos es un hito trascendental en la historia democrática de euskadi eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor hernández efectivamente podemos discutir sobre la aplicación de los valores que asociamos a un ideario puesto en marcha en tiempos de la segunda república

en todos los sentidos en cualquier caso me ha preguntado usted

en su primera intervención ha hecho referencia a la soberanía popular y al parlamento y en esta segunda intervención también ha dicho que van a presentar una moción en este parlamento

comienzo por poner en valor toda la labor realizada por el gobierno vasco en el ámbito de los principios y valores que usted ha citado antes tanto en el ámbito social como con el autogobierno también la labor de recuperación de la memoria histórica que ha realizado el instituto gogora que está realizando el instituto gogora

obviamente participa y además yo reconozco también su implicación en ello creo sinceramente que hoy en día el mejor homenaje que podemos hacer a aquellas personas y a aquellas políticas de progreso de los tiempos de la república es incidir en esas mismas políticas y valores que puso en marcha el primer gobierno vasco

continuar trabajando en ellas es el mejor homenaje que podemos rendir en todo caso

se sumará a las iniciativas que fueron en su caso aprobadas por esta cámara con motivo del noventa aniversario es justo reconocer a la segunda república el marco que favoreció la aprobación del estatuto vasco del día

de mil novecientos treinta y seis y en este sentido invito también a esta cámara a la reflexión en relación a esta fecha histórica

cuando este año este año se celebra el ochenta y cinco aniversario de aquel primer estatuto lehendakaria naizen aldetik egunero

trabajo y trabajamos cada día por una sociedad vasca más justa solidaria e igualitaria

todas y todos somos necesarios y también corresponsables la pandemia que usted ha citado también en relación a lo que pueda condicionar cualquier acto que podamos

del noventa aniversario también con la mirada puesta en el ochenta y cinco aniversario del primer estatuto el uno de octubre

y en los difíciles momentos que vivimos tenemos la oportunidad de dejar constancia práctica noventa años después de que sabemos atender lo mejor delegado y los valores

sumar y colaborar en favor de toda la sociedad eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera

mucho y que es un tema de primer orden y es la gestión de las residencias y los escándalos que se han derivado de las mismas acostumbramos a preguntarle a la consejera pero bueno hoy le toca a usted

nos ponemos a gestionar desde posturas poco humanas y poco dignas cuestiones que son profundamente humanas y es lo que ha sucedido con la privatización de las residencias

kudeatzen ari da no se cuida la vida sino que se gestiona gerencialmente la vejez es sencillo negocio con la vida

eta heriotzarekin espekulazioa la dependencia es el nuevo nicho de mercado así que

se dan fondos buitre y a facturar esto enfada duele y preocupa muchísimo trece residencias en euskadi gestionadas por una empresa detrás de la que hay fondos buitres domus vi podrían estar llevándose comisiones por derivar

el gobierno vasco tiene una figura que se llama la alta inspección

eskandalua eta prekarietatea y hay varios datos no las cifras de personas muertas no son las mismas si las dan las diputaciones o las da osakidetza

si las hacen las asociaciones de familias o si las hacen las diputaciones las trabajadoras llevan años denunciando la precariedad de sus condiciones las asociaciones de familiares como babestu

llevan pidiendo tiempo que se les atiendan y que se atiendan sus demandas y no se les atiende las mociones y propuestas que presentamos desde nuestro grupo en juntas generales y aquí mismo

la gestión de las residencias por las diputaciones tres modelos distintos tres disparidades de criterios desconfianza y el liderazgo del gobierno vasco en toda esta situación ausente

ausente también pero bueno yo creo que hay que volver al tema de domusvi que es uno de esos escándalos que ha saltado ahora a los medios de comunicación y que no solo es eso es que está acumulando denuncias en todos los territorios sabemos y vemos que ustedes no hacen nada

me puede confirmar que es rotundamente falso el escándalo de domusvi deberían mostrarse proactivos y algunas ideas investigar a esas empresas comprobar que no incurren en la vulneración de derechos de las personas residentes ofrecer garantías de que no se va a repetir y hacerlo además urgentemente

quién cuida que cuiden ustedes que cuiden las instituciones públicas que cuiden dignamente y con condiciones con derechos

cuidar es también política eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora gonzález no confunda usted o no mezcle lo que es la ley doce barra dos mil ocho con lo que es el decreto

no confunda usted tampoco en su intervención en su referencia al conjunto de las instituciones con lo que es la competencia

y es a las diputaciones forales a las que compete la inspección

les compete identificar incumplimientos de la normativa y adoptar las medidas pertinentes la responsabilidad que compete al gobierno vasco se desarrolla en el decreto doscientos ochenta y tres barra dos mil diez de la alta inspección que usted menciona

garantizar el ejercicio efectivo del derecho subjetivo y atender los aspectos relativos al acceso a las prestaciones y servicios de la cartera de servicios sociales

durante este tiempo de pandemia ha habido una comunicación y colaboración permanente del gobierno vasco con las diputaciones forales competentes en los centros residenciales

con los diputados generales como la consejera de salud como la consejera de igualdad justicia y políticas sociales con los diputados de acción social hemos mantenido una relación permanente la contención de la propagación del virus y la correcta atención y el bienestar de las personas mayores

de la actuación de todas las instituciones hemos avanzado mucho y hemos aprendido mucho

ha revertido en la mejora de la atención y la calidad de vida de las personas en las residencias y tenemos que seguir mejorando sin duda

planteé la nueva estrategia sociosanitaria como uno de los puntos de encuentro para avanzar en la colaboración es una cuestión interinstitucional

y el servicio que ofrecemos a las personas mayores en el presente y en el futuro

estoy convencido de que si ha habido algún tipo de mala praxis por parte de esta empresa mencionada u otras empresas

esto es el ministerio de derechos sociales y agenda dos mil treinta del gobierno español las diputaciones forales y la fiscalía que se encuentra investigando emprenderán las acciones necesarias

gracias presidenta buenos días lehendakari vicelehendakari consejera señorías bien esta interpelación que vuelve a tratar un tema

sobre economía social pero desde otro ámbito

podría tener una doble vertiente además la primera la que responde literalmente al interrogante de la iniciativa esa posibilidad de creación de un consejo vasco de la economía social y la segunda también a la participación de nuestra

en el recientemente reactivado consejo para el fomento de la economía social a propuesta del ministerio de trabajo y economía social en este consejo que acaba de reactivarse se regula la participación espero que

de nuestra comunidad autónoma en los trabajos e importantes funciones asignadas por ley al mismo y en este caso por real decreto al consejo

todos sabemos desde luego lo que es la economía social lo que la ley cinco barra dos mil once dejó muy claro ese conjunto de actividades

que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades de conformidad a una serie de principios muy claros primacía de las personas y del fin social sobre el capital

solidaridad interna etcétera persigue bien de interés colectivo de sus integrantes o bien general económico y social o sea que en ese sentido conocemos esa expresión y esa definición y sabemos que

a la práctica de todas las expresiones de la economía social hay presencia en el país vasco de todas en mayor o menor medida forman parte

las mutualidades las fundaciones las asociaciones que llevan a cabo actividad económica las sociedades laborales las empresas de inserción

por normas específicas en relación con esos principios de los que hemos hablado o sea que además muchas de estas expresiones de las que hemos hablado

confederaciones incluso tenemos además un importante entramado de empresas y entidades de economía social tenemos instituciones en el ámbito universitario que se dedican a estudiar la dimensión

económica de este sector tan importante en nuestra economía disponemos de un observatorio vasco de la economía social que analiza la realidad últimamente ha habido una ralentización sin duda alguna por la situación actual en este último año en relación con algunos indicadores algunas magnitudes a identificar pero

que recientemente también tenemos que decir ha publicado un informe

acompasado de cómo se va desarrollando esta forma de economía también en ese ámbito y ese informe las mujeres en la economía social y solidaria demuestra que es así

entidades ejes se llama asociación vasca de economía

que aglutina a las organizaciones más importantes de la economía social en euskadi konfekoop

que es esa esa asociación por eso nosotros planteamos con esta interpelación es una reflexión por aglutinar estos ámbitos que hemos referido estos ámbitos académicos o asociativos o empresariales

con características y funciones institucionales y de asesoramiento consulta promoción sobre todo difusión fomento de la economía social puede ser esto una cuestión procedente interesante y por eso realizamos interpelación la ley cinco barra dos mil once de veintinueve de marzo de economía social regula por otro lado en su artículo trece el consejo para el fomento de la economía social

el consejo para el fomento de la economía social estará compuesto por representantes de la administración general del estado de las administraciones autonómicas y o asociaciones entidades locales etcétera etcétera por otra parte el más importante el propio consejo de ministros de veintiuno de febrero de este año acordó reactivar el consejo para el fomento de la economía social

su labor ese artículo ocho también de la ley cinco barra dos mil once regula el fomento y la difusión de la economía social de la ley referida y dice que en el desarrollo de las actividades de fomento de la economía social se respetarán las competencias de las comunidades autónomas

al respetarse esas competencias perfectamente se ve que esa vinculación a un consejo vasco pues puede ser

realiza esa vinculación para el asesoramiento de las consultas a un consejo

se impulsarán los mecanismos de cooperación y colaboración necesarios con las administraciones autonómicas para el desarrollo de las actividades de fomento de la economía social bien para nosotros está claro que tanto la participación por parte

en el referido consejo de economía social reactivado ahora después del real decreto y al amparo de la ley cinco barra dos mil once y en eso podemos hablar y desde luego entendemos lo mejor representado en nuestra comunidad autónoma pues para influir porque nuestro peso dentro de la economía social en españa

no digamos nada en el sector cooperativo pero en los demás también y por eso esta participación en el referido consejo como la posibilidad de constituir

vasco de fomento de la economía social son cuestiones que para este grupo se presentan como importantes de cara a las posibilidades que las empresas las entidades de la economía social

en el futuro no en el marco de esa amplia regulación y de ese amplio concepto

pero amplio por ello a la vista

hemos planteado esta interpelación a la señora mendia

el fomento de la economía social a través de la creación en el país vasco de un consejo vasco de la

al amplio sector existente está bien claro que las interpelaciones hay que

indica el reglamento no puede haber dos expresiones en relación con esas cosas nosotros aglutinamos un poco la posición del gobierno en relación con esta cuestión y también la de la participación
en el consejo de fomento de la economía social de españa muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko

agindua da porque en euskadi hemos sabido hacer el camino de la economía social y de la participación de las distintas organizaciones en la toma de decisiones y usted lo sabe porque

lo venimos haciendo desde el año ochenta y dos con la primera ley de cooperativas allí ya previmos que hubiera un órgano de promoción y representación de las cooperativas y de sus organizaciones

en mil novecientos noventa y seis se creó la confederación de cooperativas de euskadi y el consejo superior de cooperativas de euskadi pasa a centrar sus esfuerzos en la realización de las funciones

no se ha reactivado como usted ha dicho en su interpelación se ha puesto en marcha este consejo es pionero en españa es una entidad pública de carácter consultivo y asesor de las administraciones públicas vascas pero sabemos que las cooperativas no son la única forma de economía social por eso

de la pasada legislatura lo incluimos en el programa del gobierno vasco para esta legislatura y usted propuso que esta cámara además lo avalase hace escasamente tres semanas como usted mismo ha citado en su intervención y para llegar a ese plan antes

con todas sus familias y tipologías y todo esto usted lo sabe muy bien señor barrio pero ha querido hoy traer al menos dos buenas noticias a esta cámara y eso es bueno es viernes y es bueno que traigamos buenas noticias a esta cámara

sigue el camino que abrimos hace tiempo en euskadi y donde le damos la bienvenida y que el pp supongo que también ciudadanos en este caso está muy de acuerdo con el gobierno de españa es una buena noticia y tal vez usted señor barrio nos traía hoy aquí en su pretensión un debate estrictamente sectorial y en realidad pues nos quieren enviar un mensaje de mayor calado político

sí gracias presidenta gracias señora

vicelehendakari por qué no voy a estar de acuerdo con el gobierno de españa en relación con el cumplimiento de las leyes

ordinario de la ley cinco barra dos mil once que establece el consejo de fomento de la economía social y la participación de las comunidades autónomas en ese consejo de fomento de la economía social

que tengo que estar de acuerdo la última

de trabajo del partido popular además fue la que impulsó

el plan estratégico de la economía social para españa todavía en vigor ahora será sustituido

desde luego mi grupo parlamentario y los partidos que lo componen estamos totalmente de acuerdo con el impulso y fomento a la economía social en todas sus

sí que es reactivación porque ese consejo ya estaba regulado antes otra cosa es que no funcionase pero de alguna manera es una reactivación pero en cualquier caso muy bien pues que se constituya definitivamente y que vaya por ahí no y nosotros por eso le habíamos hecho

o la reflexión que yo le planteaba sobre un consejo vasco de fomento o asesor de la economía social podía ser

a lo que la ley de cooperativas habla del consejo superior de cooperativas el consejo superior de cooperativas efectivamente tiene una misión que cumplir muy importante en relación

con el conjunto de la economía social que es mucho más amplio es muy importante nosotros también aportamos en la última

claro que sí apoyamos apoyamos la última ley de cooperativas trabajamos intensamente además por enriquecerla y en ese sentido pues ahí está nuestro planteamiento

y lo que es el consejo de fomento de la economía social tendría otra

o a sus asociaciones y federaciones o confederaciones con la actitud institucional o sea que yo creo que y además le tengo que decir que yo no le estoy pidiendo porque en otras comunidades ya hay no una ley vasca de la economía social que estaría muy bien

pero por ejemplo y se lo aconsejo que le eche un vistazo que seguramente lo habrán hecho o su equipo

donde también establece un consejo gallego de fomento de la economía social muy interesante además que vincula a todo el sector es decir o el consejo andaluz de la economía social también o sea más allá de las propias cooperativas que tienen el suyo uno más amplio que sea regulado por decreto o

o el consejo asesor de la economía social en murcia o ese proyecto de ley que ahora un partido como el suyo impulsa en aragón en relación con la economía social donde también va a haber

un consejo de fomento de la economía social o en asturias

es del sector público impulsada por el gobierno también en este caso por un gobierno socialista es decir que comunidades autónomas con

tienen ya articulado ese mecanismo yo vamos yo creo que es una buena reflexión se le propongo como reflexión y como análisis porque yo creo que es

un sector de la economía social fuerte en sus variedades

más que otras pero representadas todas y puede haber un marco teórico práctico de actuación de consulta de asesoramiento de fomento de cooperación en la economía social por eso mismo quiero decir

de españa de este último y de los anteriores vuelvo a decir de todos los anteriores porque todos han ido evolucionando en relación con

puede faltar una pieza puede faltar una pieza en relación con esa cuestión

bueno estando en lo sustancial de acuerdo

esta comunidad autónoma desde luego en el ámbito de la economía social bien sean cooperativas bien sean sociedades laborales bien sean empresas participadas

que se mira desde muchos lugares de españa y de fuera de españa evidentemente siempre tenemos que seguir avanzando pero tenemos que hacerlo yo al menos así lo veo de la mano

y a mí lo que me sorprende y se lo decía en el primer turno señor barrio es que hace escasamente usted tres semanas nos trajo aquí una interpelación también una iniciativa sobre el plan estratégico interdepartamental de economía social que el gobierno vasco está empezando ya

y que tiene que ver no solo con un diálogo interno dentro del gobierno sino con un diálogo con los sectores a los que se quiere dirigir este plan y además se lo vamos a traer al parlamento sometido a debate monográfico para que los grupos de la cámara puedan hacer sus aportaciones a través de propuestas

en todo lo que tiene relación con la economía social y esa reflexión que usted plantea la tenemos que analizar dentro del plan estratégico

me llama la atención es que escuchándole a usted yo no sé si usted ha hablado realmente con los protagonistas de la economía social la que no

para presentar esta iniciativa porque nosotros desde el departamento llevamos trabajando con el sector codo con codo muchos años

su demanda más intensa y ahí les hemos acompañado en todo momento y les seguimos acompañando al sector desde el gobierno vasco es la modificación de una ley estatal la ley cuarenta barra dos mil quince de sociedades laborales y empresas participadas y ellos es en lo que están quieren desarrollar eso y no solo

de la economía social vasca sino también a nivel de toda españa es una reivindicación que han puesto encima de la mesa del ministerio y que yo en todas las ocasiones en las que he podido hablar con la ministra de trabajo le he puesto ese tema encima de la mesa con un trabajo además desarrollado por el gobierno de acuerdo con el sector exactamente lo que demanda el sector y yo creo que nosotros

ni a golpe de moción ni a golpe de proposición de ley pero es que tampoco creo que el gobierno tiene que ordenarlo a golpe de decreto esta cuestión que usted plantea hoy puede resultar interesante

en el marco del plan estratégico y por supuesto en el marco también del diálogo con otros grupos políticos que en esta cámara seguramente aportarán

en el tiempo en el que traigamos el asunto

aunar esfuerzos contribuir todos y creo que en eso en euskadi todas las instituciones están alineadas en el desarrollo y en la apuesta por la economía social

que pone a la persona en el centro que para su mayor prioridad es la calidad en el empleo el vector de la igualdad está permanente por lo tanto es una apuesta clara del ejecutivo por su programa de gobierno pero también por una larga trayectoria de trabajo de la mano con el sector y de compromiso con la economía social yo hace escasamente unos días presentaba precisamente de la mano

un proyecto para desarrollar la economía de los cuidados en euskadi desde el punto de vista de los perfiles del empleo por lo tanto están muy presentes en toda la acción

del gobierno vasco así que por terminar señor barrio yo como le decía al principio me alegro mucho

así que yo creo que entre ustedes también se tienen que poner un poco de acuerdo porque unos critican mucho al gobierno de españa y otros pues vienen aquí a aplaudir y realmente yo espero que este tema de la economía social lo tratemos con seriedad

podamos seguir acordando en esta cámara como hemos acordado todas las cuestiones relacionadas con la economía social por unas amplísimas mayorías cuando no
yo invito a la cámara a que ese debate se desarrolle con ese clima de voluntad de acuerdo y de trabajo por la economía social eskerrik asko eskerrik asko mendia andrea

langileei eta pandemia aurrean aparteko erantzuna eman zen y gracias a esa respuesta excepcional que se dio desde osalan

gracias al trabajo y los planes de prevención realizados codo con codo con los sectores para la puesta en marcha gracias eskerrik asko mendia andrea

pero los datos dados a conocer por la mayoría sindical son lo suficientemente graves como para que la siniestralidad laboral sea cuestión prioritaria

y es lo que hasta ahora no vemos en su gobierno esa centralidad gainera laneko istripuei buruzko datu hauek agerian uzten dute prebentzio sistema

para que sigamos teniendo la siniestralidad laboral y este incumplimiento seguirá

medidas algunas con carácter urgente y valiente en torno a tres cuestiones una promover empleo con derechos porque solo el empleo digno y decente protege

en la necesidad de derogar la reforma laboral dos control eficaz y sanciones a las empresas infractoras esto exige reforzar la inspección de trabajo estamos muy lejos del ratio que establece la oit de una persona inspectora por diez mil personas trabajadoras en nuestra comunidad ese ratio se triplica

las diez contrataciones acordadas por su gobierno y por último la tercera

y salud laboral para ello es necesario abordar también los niveles de autogobierno porque no se puede decir un día que no toca hablar de autogobierno porque hay que dedicarse a la crisis

porque la competencia para decidir sobre este tema está en madrid eta bukatzeko

tenemos que tener claro cuando nos aproximamos a un tema tan sangrante como la siniestralidad laboral o la prevención de riesgos laborales es la seriedad con los datos si no tratamos viene el dato no podremos alcanzar conclusiones que sean válidas

por lo tanto esa es la primera reflexión que me gustaría hacerle y desde luego hay que partir de la realidad y la realidad es que la competencia para crear las plazas de la inspección de trabajo compete al estado al gobierno de españa y ahora que ustedes participan tan activamente de la política

para que saquen una ope cuanto antes con respecto a los inspectores de trabajo que nosotros tenemos los deberes hechos dentro del gobierno para que esas plazas sean cubiertas a la mayor brevedad desde luego la excusa del covid no me parece la más adecuada para el totum revolutum de datos que usted ha traído aquí

yo creo que tenemos que partir como le decía de la seriedad en los datos y desde luego decirle con claridad que para el gobierno es un drama cualquier accidente y desde luego un muerto

dato aunque solo hubiera uno pero cada accidente es una tragedia y cada accidente se investiga se sanciona si no se ha cumplido

y las estadísticas como le decía tienen que servirnos para poder diseñar las mejores políticas y osalan en ese sentido trabaja con unas pautas con unas series históricas que permiten seguir el número de siniestros sus circunstancias investigarlos poder prevenirlos y también lo mismo con las enfermedades y lo hace sobre los trabajadores vascos en empresas radicadas en euskadi porque yo por el número que usted ha dado entiendo que no se está ciñendo a esos criterios que se siguen

tenemos que tener las mismas series si no no sirve la comparación y lo cierto es que la incidencia de accidentes de trabajo en todos los sectores en el año dos mil veinte ha bajado y eso

que es pública y accesible para todo el mundo y por último decirle que

osalan nace con la vocación de la prevención de los riesgos laborales y de la prevención de las enfermedades laborales diseñamos planes de prevención con la implicación de todos los agentes con empresarios con los delegados de prevención y con todos los sindicatos que se quieran sentar en el consejo de osalan yo por eso aprovecho hoy también para invitar a aquellos sindicatos que pudiendo estar en el consejo de osalan participando del diseño de las políticas de prevención deciden quedarse fuera

de manifestar hoy aquí su posición pero creo que el lugar que les corresponde es allí en el diseño de las políticas asumiendo también las responsabilidades así que decirle por último que con la enfermedad profesional y con la siniestralidad lamentablemente no vamos a acabar por decreto

porque hasta este mes marzo de dos mil veintiuno ningún dictamen desde agosto de dos mil diecinueve con un cambio de gobierno y numerosos nombramientos en cargos de confianza por medio

pero más preocupante o grave que el mal funcionamiento o inoperancia de la comisión son las características y el sentido de los sesenta y ocho dictámenes emitidos hasta la fecha desde dos mil trece

de la mayoría de las denuncias sustanciadas quizás tenga que ver entre otras cuestiones la composición de la comisión con tres miembros del propio gobierno sobre los cinco que la componen muy lejos de los estándares europeos para este tipo de órganos y ahora

tienen sobre la mesa al menos dos asuntos para dirimir llevan un año con las persistentes adjudicaciones de gogora encabezada por aintzane ezenarro a montai

pero atendiendo a los precedentes ya sabemos en qué dirección irán estos dictámenes en la de eximir

y es que a nuestro entender señora garamendi y llegados a este punto ustedes tienen dos opciones una o disolver la comisión y poner por ejemplo una oficina de buenas prácticas independiente siguiendo el modelo de los países europeos en marcha o dejar de confundir a la ciudadanía vasca y llamar las cosas por su nombre no lo llamen comisión de ética llámenlo comisión de estética

ikusi eta entzun ditugu incluso por parte de los partidos que forman parte de este gobierno

que en el caso de la naval lloráis con lágrimas de cocodrilo

es responsabilidad del partido nacionalista vasco y del partido socialista de euskadi con arantxa tapia consejera de desarrollo económico como principal responsable

de una opción ideológica neoliberal que se ha basado en la mínima intervención pública del estado como no les gustan los neoliberales y en este caso

y eludir hacer omisión de sus responsabilidades de liderazgo de la política

a solucionar el problema y como ya hemos dicho dijimos en su momento

esperando a godot ese inversor mágico que vendría con la chequera a recuperar el proyecto y godot no apareció ha desaparecido y ahora se asustan de las consecuencias de sus actos o de sus no actos en una puja al mejor postor por liquidación y derribo

el mejor postor y si no se ha sido capaz en ningún momento de articular

son las que son podía haberse evitado la naval no era una causa perdida desde el punto de vista empresarial no es una empresa que murió de inanición

con la cartera de pedidos llena trabajando y con perspectivas de trabajo a medio y largo plazo a la cual una mala gestión

de quiebra financiera pero que evidentemente tenía mercado y posibilidades de haber salido adelante y ahora nos llega el típico recital de este gobierno espero confío deseo espero que se mantenga la actividad industrial confío en que haya un proyecto deseo que siga habiendo industria

el gobierno está para hacer para eso es el poder ejecutivo y aquí no ha hecho y consecuencia de no hacer es el cierre definitivo de la naval y la posibilidad de que sus terrenos se conviertan

y omisiones de este gobierno que son las que nos han conducido a la situación actual

como se ha hecho en escocia y como se ha hecho en francia rescates públicos de astilleros el partido socialista de euskadi y el pnv fueron incapaces de encontrar un inversor privado que asumiera la continuidad del astillero incapaces de encontrar un inversor privado

la posibilidad de una sociedad público privada para hacerse con la gestión ni de encontrar un socio privado para participar junto con el gobierno vasco quizás porque no tenía ninguna gana de participar ni tampoco de impulsar la creación desde el sector empresarial vasco

del gobierno vasco en este proyecto de reflotar la naval

la primera fase del procedimiento concursal antes de que se vendiera

y se podía haber comprado a precio de derribo pagando prácticamente

del astillero con la seguridad social por menos de diez millónes se podía haber adquirido y aunque no hubiera sido el propio gobierno el que lo hubiera puesto en marcha tendría la garantía de que cualquier proyecto ahí

de la aceptación por parte del gobierno y por tanto tener ese carácter

el pnv y podemos en madrid rechazaron una enmienda a los presupuestos generales del estado

precisamente habilitar una partida de diez millónes para la compra en esta fase del proceso concursal del astillero y ahora se quejan y ahora esperan desean y confían

cuando han tenido ustedes tiempo de sobra y han tomado todas las decisiones en el sentido equivocado señora tapia

un mes de marzo para enmarcar quiere poner torres de doscientos metros en un espacio protegido quiere abrir una acería en medio de un pueblo quiere perforar

parece que está usted preparando el currículum para presentarse al premio atila se ha metido en todos los charcos pero justo no en el de la naval usted ni es alcaldesa general de este país ni debería ejercer como lobista del sector gasero

y en la naval no lo ha hecho no lo ha hecho ha fracasado estrepitosamente

y si hablamos de presente y de futuro creo que en primer lugar tenemos que manifestar nuestro máximo respeto al procedimiento concursal que se enmarca en el ámbito judicial y las instituciones públicas en este momento todavía cuando no es firme la adjudicación no podemos ni debemos interferir en el mismo

no ha sido porque no han existido opciones han existido opciones también en la primera fase pero también había otras dificultades que le decía que no solamente

sospechosa a su juicio de contarlo de forma parcial también lo decía el máximo representante de un sindicato que estaba presente en la naval y por tanto bueno

exista el proyecto industrial que tiene que existir en ese ámbito desde luego

de una forma intensa pero dados los antecedentes históricos que existen y que usted mencionaba existe ya una voluntad y un acuerdo firme lo comentaba también

de esta semana creo que ha sido el diputado general de bizkaia entre la diputación

no solo de no recalificar esos terrenos sino de garantizar que los usos que existen en este momento en el planeamiento urbanístico que son en su mayoría industriales se garanticen con el nuevo proyecto que se va a llevar adelante está a punto de concluir el procedimiento concursal

voluntad de colaborar en la medida de las posibilidades una vez el adjudicatario sea adjudicatario en firme de

en alguna de las alternativas presentadas en las más de diez alternativas presentadas vocación de continuar con la actividad naval con la actividad de construir barcos actividades asociadas al sector naval y que podamos garantizar la existencia de esa posibilidad a futuro con el nuevo adjudicatario hemos mostrado nuestra plena disposición se lo mostramos antes a cualquiera

que sí eran opciones ganadoras opciones industriales como lo eran la mayoría no todas desde luego el gobierno vasco estará ahí para no solamente poner sus herramientas a disposición

en esa iniciativa si fuera necesario pero usted comprenderá que en un momento en el que el procedimiento concursal tiene más de diez opciones abiertas no es lícito que el gobierno vasco se pronuncie por una en concreto sino que tras la adjudicación

lo que vamos a hacer no podemos ni debemos permitirnos dinamitar ninguna opción tenemos que trabajar de forma conjunta para que la opción que se vaya a desarrollar sea la mejor para la margen izquierda y para el desarrollo de todo ese ámbito que es un ámbito extraordinario y una clara oportunidad de actividad económica

señora tapia yo perdone que se lo diga con crudeza bueno sabe que no tengo

pero es que en este tema usted para mí tiene crédito cero crédito cero con este expediente de los últimos años cada vez que

es que lo tienen ya lo tienen atado lo tienen atado y estamos diciendo cuándo lo presentará o

con todo el tiempo que han tenido con todas las opciones distintas que han tenido para articular un proyecto en tiempo y forma para salvar la actividad naval en la naval que me diga ahora que bueno ahora empezarán a ver qué se hace es que no me creo nada no me creo nada

y hasta que se vea no la obra sino la inauguración de la actividad industrial que allí no me lo creeré porque ustedes han perdido el crédito

y además es verdad que en una parte sí que estamos coincidiendo porque no me ha negado la mayor es decir yo lo que he

que un inversor privado desde su fe neoliberal

la falta de proactividad del gobierno vasco no ya a la hora de buscar

otro tipo de alternativas también con el sector privado como se han hecho en otras ocasiones como se han hecho en otras ocasiones cuando se existe una necesidad y dentro del marco de la legalidad se puede crear una alianza y había informes los trabajadores tienen informes

y aquí la diferencia es que ustedes han esperado a un liderazgo privado en lugar de actuar desde un liderazgo público que pudiera tener también cabida para un sector privado que compartiera claro el resultado es que les ha fallado por ahí y como les ha fallado nos ha fallado y nos hemos quedado sin astillero

cíclicamente está en problemas si hubiera sido una situación de estas que usted conoce que hay empresas o sectores que realmente están como están y no

el darle un año o dos de vida pero un astillero que tenía una posibilidad de un contrato simplemente con la renovación de la flota de valor para durar años ahí es que esto es lamentable

ahora estamos como estamos porque ha habido muchas oportunidades durante varios años de hacer las cosas de otra manera y no se ha hecho incluso

es que la última fase del proceso concursal es poco menos que una subasta

se liquidan los activos a cachos en lotes y el que más paga se lo lleva

pero en fases anteriores también había una predisposición a que se presentara un proyecto que diera continuidad

beraiei ez dagokiena la empresa que ha venido aquí

o actividades industriales ligeras que poco menos que son almacenamiento y transporte tenemos un reto colectivo y ahí sí vamos a estar buru belarri buru belarri baina egia esan

ustedes en la aplicación de la doctrina neoliberal son más papistas que el papa eso de que tiene que ser un inversor privado el que llegue primero no se lo creen ni los liberales en francia
ni la cdu en alemania ni cualquier gobierno que tenga aprecio a su sector industrial eskerrik asko casanova jauna bukatu da denbora

eta bakoitzak bereak har ditzala en cuanto como voy a tratar de hablar de futuro que creo que es lo que nos preocupa a usted y a mí creo que eso lo compartimos bueno en estos momentos cuando se produzca ya la adjudicación definitiva que es cierto en la segunda fase es una mera subasta es precio no es proyecto es precio pero lo sabíamos lo sabíamos cuando pusimos en peligro la primera por tanto vamos a ser claros no nos vamos a llamar ahora a qué susto me he llevado porque era así los proyectos

la empresa que hipotéticamente va a ser adjudicataria vgp que ha hecho público y que usted conocerá sin duda dice dos cosas que le preocupaban una

con enfoque principal en las actividades industriales porque conoce cuál es el planeamiento urbanístico de sestao

para preservar algunas de las características icónicas del antiguo astillero luego bueno al menos existe voluntad y además es voluntad escrita para lo que pueda valer en segundo lugar dice

vgp ha desarrollado muchos proyectos comparables al de la naval en bilbao y el objetivo principal siempre ha sido servir principalmente a empresas locales e industrias tradicionales con nuevas instalaciones modernas y de vanguardia

de las empresas que ya lo están haciendo y solamente reiterar cuatro mensajes uno las instituciones públicas hemos trabajado desde el principio y lo vamos a continuar haciendo

y la ubicación en la que se encuentran todos esos terrenos la parcela con clara vocación industrial aunque no exclusiva en el planeamiento tiene que garantizar que la actividad sea de esas características

además bueno prioritariamente vocación industrial asociada a la industria del

apostamos por las conversaciones privadas que conocemos que ya existen entre empresas privadas que están interesadas en continuar con la actividad y la potencial

para que se lleve a cabo el proyecto que se pueda llevar a cabo en esas condiciones

y finalmente disposición de las administraciones vascas todas de reunirnos con la propiedad por supuesto cuando lo sea cuando acabe el proceso
concursal y con las empresas interesadas para llevar a cabo el mejor proyecto y desde luego con nuestra máxima colaboración eskerrik asko eskerrik asko tapia

en venta esta empresa desde luego uno de los elementos principales es conseguir que la operación sea la mejor posible

la pandemia no ayuda pero la operación mejor posible usted sabe perfectamente cuál es la que definimos desde luego en esta cámara creo que podemos estar de acuerdo todos en que sea

de crecimiento de arraigo de generación de empleo de continuidad con

podemos poner muchísimos calificativos y esa es la operación importante es decir que

actual vendedor de la empresa en esta operación entienda que eso es lo relevante estamos en esa operación trabajando con el estado tratando de que esos sean los parámetros principales las características de la operación más allá quién va a ser si va a ser una empresa si va a ser otra

muy precipitado hablar de ello hay que tener un poquito de tranquilidad y sobre todo un poco de discreción y en el sentido de si el gobierno puede participar ayudar en esa operación exactamente lo mismo que le he dicho

sí pero siempre que exista una opción importante que garantice estas características eskerrik asko

apoya esta operación deberían buscar una entrada en el capital que le dé capacidad de intervención en las decisiones de la nueva empresa garantizando la orientación social de la misma en segundo lugar recordamos que el sector aeronáutico es uno de los principales generadores de gases de efecto invernadero

a la fabricación de motores debe ser apostar por líneas de eficiencia energética enfocadas con la necesaria transición que debe abordar el sector aeronáutico en tercer lugar

y creemos que la opción como país es transitar hacia otro modelo

debería reenfocar su actividad de forma progresiva hacia el ámbito de la aeronáutica civil y en cuarto lugar pero no por ello menos importante sino quizás en estos momentos por lo menos en esta coyuntura un factor a resaltar y a poner en primer término aunque lo haya mencionado el último es que la nueva empresa debería comprometerse con el empleo y con la calidad asumiendo la necesidad de revertir los despidos producidos en los últimos meses cuando he entrado aquí me han dado un papelito en el que decía los trabajadores

y los despidos qué y me ha llamado la atención uno de los lemas que

muchas gracias señora presidenta consejera consejero señorías buenos días de nuevo señora tapia le tengo que hacer esta pregunta hicimos desde mi grupo parlamentario dos solicitudes de información a su departamento sobre las relaciones comerciales entre tekniker y vicomtech fundaciones en la que participa el gobierno vasco

empresa navarra que fue un fiasco económico con sentencias declarando culpable el concurso de acreedores y con graves consecuencias políticas en el gobierno navarro y un impresionante agujero económico

mucho dinero en sus relaciones con este proyecto industrial fallido

información y no nos respondió y le voy a recordar su postura en relación con este tema es decir en otra respuesta usted nos dijo que al patronato donde están ustedes representados le

de los datos generales y de las cantidades que se deben aprovisionar por los proyectos fallidos y ustedes están allí es

de marzo a dos solicitudes de información como le digo sobre las relaciones comerciales de

fueron absolutamente insuficientes fueron la nada y faltas de sobre todo de la

cuando el parlamento le pide información de la que debe disponer ambas fundaciones tienen en su patronato representantes del gobierno vasco y sin embargo

facturas objeto de impago documentos que formalizaban prestaciones

y el gobierno diciendo que podría tener acceso a la información relativa a la gestión de las fundaciones pero no disponía de esa documentación eso señora consejera es que es increíble
participan en el patronato y no dispone de la información pues yo se la exijo señora consejera eskerrik asko barrio jauna tapia andrea zurea da hitza señor barrio esto ya lo hemos hablado

las dos fundaciones son fundaciones privadas sin ánimo de lucro eso sí es verdad en cuyo órgano de gobierno

participa el gobierno vasco cada uno de ellos está compuesta por diecinueve patronos el gobierno es uno de ellos

usted comprenderá como en otras empresas las relaciones y los acuerdos y el trabajo en aras de un buen gobierno corporativo también en estas fundaciones privadas se lleva a cabo por tanto no estamos ante una excepción de ningún tipo

está presente y lo dijimos la otra vez participamos en la preparación en la aprobación de todo lo que es el plan estratégico y el seguimiento anual

se auditan y también le di cuenta de esto pero desde luego no disponemos ni de este ni de ningún otro de los miles de contratos que hacen las fundaciones privadas

en aras a desde luego concretar y participar en un buen gobierno corporativo desarrollamos nuestra tarea en cuanto al plan estratégico

proyectos como este que han resultado fallidos que han tenido problemas se auditan esas cuentas y se lo dije la pasada vez cuentas auditadas sin ningún problema en las mismas las dos fundaciones han tenido ganancias todos los años

en estos contratos y en algún otro porque no son los únicos contratos que han causado pérdidas han estado concretamente provisionadas y bien organizadas insisto
cuentas auditadas sin ningún problema eskerrik asko tapia andrea barrio jauna zurea da hitza

es que no es excusa es decir participar en un gobierno corporativo no es sinónimo de oscurantismo y de falta de transparencia me gustaría haber sabido que sí que le había pedido después de la solicitud de información y de la respuesta pero no

en qué se pierde el dinero de las empresas en las que participan pues a nosotros sí nos interesa

se pierde el dinero de las empresas en las que en las fundaciones en este caso donde está representado el gobierno vasco saber en qué ha perdido tekniker más de dos y medio millónes de euros

ciento sesenta y tres mil euros creo que es nuestra obligación interesarnos por ello señora consejera recibir la información

que complete la información solicitada con la información requerida es el más exigible de los derechos de información al parlamento y de transparencia y privada sí por supuesto que es privada y en estos casos y en esos documentos en esos contratos fallidos es decir con otras empresas de otra comunidad autónoma pues participa

esos patronatos de las fundaciones el gobierno vasco y en el año dos mil diecinueve además

hay una especial vinculación en todas estas cuestiones y nosotros tenemos que saber y además es de una cuestión con davalor sl que figura en un proceso judicial

así que no me puede venir con cuentos señora consejera eskerrik asko barrio jauna tapia andrea zurea da hitza

es pretender mezclarlo todo y tratar de echar la tinta del chipirón a ver hay dos contratos con dos centros tecnológicos dos fundaciones privadas que han contratado con una empresa que no es del territorio contratos privados que desde luego en los patronatos se ha analizado la situación de las cuentas anuales

que han sido fallidos pero de todas maneras están correctamente provisionados y las empresas tienen sus cuentas auditadas usted me puede pedir todos los contratos todos de una fundación que es pública que es neiker pídame usted todo lo que quiera pero desde luego en ninguna otra

puedo yo disponer de esos contratos ni los tengo ni es necesario que los tenga para realizar mi labor como gobierno y como patrono de la forma más adecuada posible por tanto empresa que vino a euskadi a poner en marcha un proyecto de investigación

existió resultados y se pudo observar por tanto la labor de los centros adecuada la empresa no abonó sus facturas

que resultó fallido bueno en tantas otras ocasiones existen startups y ustedes precisamente el partido popular son los más impulsores del emprendimiento de las startups

y bueno pues se cierra una empresa grande o una empresa pequeña cuál es el problema con esta empresa concreta acaso

en euskadi y en el mundo que haya sido fallida estos centros tecnológicos han desarrollado su tarea de acuerdo con los contratos y la empresa no los ha abonado cuentas auditadas

muchas gracias señora presidenta muchas gracias señorías señor azpiazu consejero don pedro maría le han dejado prácticamente solo cuando

los demás debates también pero el verdaderamente importante es este que vamos a tener usted y yo aquí ahora

y a ver si conseguimos y cómo vamos a salir de esta hay otro debate que desgraciadamente se está produciendo fuera al que quizá luego me referiré pero yo creo que el debate importante es efectivamente este

y sobre todo cuáles son los propósitos del gobierno para hacer que las tendencias económicas que existen pues vayan en sentido contrario

hace unos días usted mismo señor azpiazu ya tuvo que reconocer en un conocido foro económico que probablemente revisaría a la baja

las propias previsiones del gobierno vasco el presupuesto que

estaba construido sobre una serie de indicadores que ya le dijimos este parlamentario ya le dijo unas cuantas veces

que no se correspondían con las previsiones establecidas por otras organizaciones que analizan también la economía básicamente se hizo un presupuesto calculando una previsión de crecimiento del ocho coma nueve luego se bajó un poquito al ocho coma seis en diciembre por parte del gobierno vasco y es que había instituciones que ya estaban diciendo que a lo mejor como mucho se crecía un cinco coma ocho o sea tres puntos menos que ahora por cierto

lo acaba de confirmar el banco de españa los indicadores económicos en primer lugar

yo no hago más que remitirme a los indicadores económicos se lo pregunté varias veces

una grandísima discrepancia entre lo que nos dicen otras instituciones y lo que nos dice el gobierno vasco me da la sensación señor azpiazu le dije en su momento que es usted excesivamente optimista hombre el optimismo está bien pero es que

y las previsiones económicas del gobierno se han construido un poco perdóneme que se lo diga sobre el cuento de la lechera le he hecho

desde finales del año pasado hasta ahora todas en el mismo sentido

que tenga bien aclararnos pues tanto cómo ve las previsiones económicas y sobre todo de qué manera pensamos hacer frente a la situación que al final nos acaba afectando a todos porque seamos sinceros

solo salimos con dos cosas vacunas que no es que lo estemos haciendo especialmente bien y reactivando la economía recuperar el empleo recuperar la actividad económica y así la recaudación la recaudación pues mire la recaudación a fecha vamos las previsiones que una vez más hizo el gobierno sobre lo que iba a ser la recaudación

fechas más o menos bueno para el mes pasado mire esto es lo que usted decía

en cambio estamos aquí según los últimos datos según los últimos datos

es verdad que la triquiñuela que suelen utilizar algunos gobiernos que es no utilizar los datos con claridad

recaudación quizá a la baja que es lo que hicieron el ejercicio pasado

como si se hubiera hecho una grandísima gestión cuando en realidad lo que pasó es que se dejaron de ejecutar un montón de partidas presupuestarias y subió un poquito la previsión de la recaudación que ustedes mismos habían dicho contra el criterio de otras instituciones que ya habían dicho que iba a subir un poquito a final de año la recaudación y entonces sacan pecho diciendo que ahora tenemos mil millónes más para hacer frente

pues es que esto desgraciadamente no nos va a servir a partir de ahora la recaudación está bajo mínimos como siga así la tendencia usted que lo sabe además tiene un gabinete que está capacitado perfectamente para calcularlo como sigamos así a finales de año se van a recaudar unos seiscientos o más o menos el efecto en el presupuesto

menos da la sensación de que todo lo que es el presupuesto la previsión en la gestión etcétera se fían a dos cosas no

es que sabemos gestionar sacamos pecho que bien gestionamos y si va mal

entonces el otro día le pregunto señor consejero señor azpiazu

oiga qué le parece la inestabilidad del precio del petróleo cree usted que la inestabilidad y la tendencia al alza del precio del petróleo afectará a la economía vasca me contesta no parece que vaya a tener una incidencia significativa en la economía vasca

hace que el gobierno se pueda replantear a lo mejor quizá a la baja sus previsiones económicas me contesta considero que las previsiones incluidas en los presupuestos

siguen siendo válidas y esto me lo dice usted con fecha de nueve de marzo que es cuando se registra la respuesta que me mandó bueno pues yo qué quiere que le diga es que negar la realidad

no nos lleva a ninguna parte porque como usted bien sabe en economía es importantísimo jugar con las cartas levantadas

y que todo el mundo sepa a qué atenernos que es justo lo contrario que desgraciadamente está haciendo está haciendo su gobierno

sí que si les dejaran podría saber hacer su trabajo pero es que me da la sensación que es que el problema que tiene es el resto de sus compañeros porque la verdad es que

el presupuesto pues se hizo el presupuesto de siempre el de siempre

claro que son presupuestos sociales pero es que eso no nos lleva a nada era un presupuesto además construido

el banco de españa el banco de españa que precisamente

acaba de revisar a la baja las previsiones de crecimiento generales para españa

el precio del petróleo el que según usted pues no iba a afectar para nada

se lo repetí varias veces lo fiaron todo al dinero europeo a la deuda

si fuéramos una empresa que está en dificultades económicas y fuesemos a pedir un crédito a un banco

si fuéramos una empresa que va a pedir la ayuda al gobierno vasco

porque es que no ha presentado ni una reestructuración ni un cambio en cuestiones fundamentales económicas ni una inversión realmente creíble

le digo que tengo en el fondo fe al menos en su conciencia por eso el otro día le mandó usted un mensaje a su socio el señor sánchez y se quejó de que efectivamente con los fondos europeos

es que claro ustedes presentaron un presupuesto sabiendo que estos parámetros sobre los que lo construyeron no se iban a cumplir pero confiaban en dos cosas bueno en tres cosas confiaban si pasa algo siempre tenemos la deuda

y luego bueno pues el dinero que venga de europa nosotros lo imputamos a cosas que ya tenemos en el presupuesto y eso que nos ahorramos por tanto

suya y de su equipo es que dependemos del dinero europeo se depende del dinero europeo

es que es muy necesario que de alguna manera se revisen las previsiones económicas y se revise lo que es la situación de actuación en el ámbito económico

están claramente superadas por la realidad el último dato que me gustaría recordarle es el relativo a la confianza de los consumidores que está bajo mínimos está bajo mínimos usted y yo lo sabemos al resto de su gobierno a lo mejor no le interesa mucho el tema pero usted y yo lo sabemos si la confianza de los consumidores está bajo mínimos eso es básicamente el indicador perfecto de la tormenta perfecta que está avecinándose una confianza

que estos no gasten no consumen por tanto no se recauda y por tanto luego no tenemos dinero para ejecutar las distintas partidas presupuestarias por todas estas razones señor azpiazu lo que

es simplemente una cosa simplemente una cosa cuáles son los propósitos de su gobierno cuáles son los propósitos de su gobierno en torno a las medidas que son necesarias para hacer frente a la ralentización del crecimiento o quizá

a la caída de la economía que se prevé para este año muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna azpiazu jauna zurea da hitza

señor gordillo a sus preguntas y a sus preocupaciones vamos a ver si lo conseguimos

que no tiene precedentes en tiempos de paz esto ya es un hecho constatado

de estadística y las organizaciones internacionales que se dedican

a pesar de ello los datos de dos mil veinte no han sido tan negativos como se esperaba hace unos meses y creo que usted considerará esta cuestión también como positiva

de este mismo mes de marzo en el que afirma que el rebote del tercer trimestre fue muy superior a lo previsto y que a pesar

a la economía permitirán una rápida recuperación de la economía mundial aunque habrá diferencias por áreas económicas y sectores

corrigió al alza las previsiones para la economía mundial el momento económico actual es de gran incertidumbre y eso está haciendo que las previsiones

cada poco tiempo no solo las del gobierno la tónica general está siendo la de rebajar el incremento esperado para el año veintiuno y elevar la previsión del año veintidós por poner un par de ejemplos los datos del consensus forecasts de marzo sitúa el consenso de predicciones

y el cuatro coma dos por ciento del próximo cuando hace tres meses la media era del cuatro coma siete para este año y del tres coma siete para el próximo las cifras correspondientes a españa actualmente son

los dos años cuando tres meses atrás estas previsiones apuntaban al seis coma uno por ciento este año y el cinco coma cuatro por ciento el próximo

es decir la idea que subyace a esos cambios en las predicciones

se traslada al próximo hace tres meses se pensaba que el pico de crecimiento se alcanzaría el año dos mil veintiuno

se extenderá casi a partes iguales entre este año y el próximo

en el calendario de la recuperación se explica por las cifras de crecimiento del cuarto trimestre que en tasa intertrimestral fueron en el caso vasco modestas y en el caso europeo

en comparación al tercero me reconforta todas formas saber señor gordillo que sigue usted de cerca el trabajo que realizamos en mi departamento

las expectativas para el primer trimestre de este año no son muy favorables a tenor de lo conocido en los indicadores de pmi de enero y febrero

sin embargo el pmi de marzo ha sido mucho mejor que los anteriores situando ya el índice compuesto en una zona de crecimiento este indicador apunta a una situación muy robusta

pero a una gran preocupación en los servicios que conforman también como sabe la mayor parte del valor añadido si se confirma un dato negativo para el primer trimestre de este año la zona euro entraría de nuevo en recesión

no al menos en la definición más utilizada de recesión que implica dos trimestres consecutivos con caídas intertrimestrales negativas del producto interior bruto otros organismos ya han publicado sus previsiones para la economía vasca y su visión aunque algo contrapuesta es muy favorable así hispalink

y un cinco por ciento para el próximo mientras que el bbva invierte las tasas y sitúa el cinco coma tres para este año

para el próximo esto significa que ambas previsiones apuntan a un crecimiento acumulado de doce puntos o incluso algo más en el periodo veintiuno veintidós

en estos tiempos tan inciertos mirar hacia el bienio puede ser una buena idea

en nuestro caso como saben las revisiones se realizan cada trimestre una vez que están disponibles

pero quiero aprovechar esta interpelación para explicarles en primicia nuestro nuevo cuadro macroeconómico para el periodo veintiuno veintidós la economía vasca crecerá este año el seis coma siete por ciento cerca de dos puntos por debajo de lo previsto anteriormente

y después de las navidades ha frenado la recuperación iniciada en el tercer trimestre

una tasa muy robusta todavía en nuestra opinión a finales del veintidós habremos superado ampliamente en más de dos por ciento

previo a la crisis en este caso lo recuperaremos en tres años

en el primer trimestre del menos dos coma cinco por ciento que mejora en cinco puntos el dato del cuarto trimestre

igual que el cuarto trimestre se anticipa un equilibrio entre la demanda interna y la demanda externa se prevé que el crecimiento del consumo privado no igualará al del pib y las familias optarán por un ahorro

al que tenían en periodos previos a la pandemia el consumo público ha jugado un papel decisivo a la hora de sostener

del cuatro coma cinco por ciento la formación bruta de capital aumentará de forma extraordinaria con tasas de crecimiento del ocho coma cuatro por ciento este año

que la recuperación de la economía vasca se apoye en mayor medida en la inversión que en el consumo facilitará un desarrollo más equilibrado

con un crecimiento del ocho coma tres por ciento una tasa que no se ha registrado en los últimos veinte años

de lo anterior en materia de empleo tendremos trece mil seiscientos personas más trabajando este año

y del uno coma siete el próximo y así la tasa de paro se irá reduciendo hasta el diez coma uno por ciento en el año dos mil veintiuno y al nueve coma cinco por ciento el año dos mil veintidós señor gordillo no se preocupe de la solvencia del gobierno el rating del gobierno sigue siendo dos niveles superiores al del rating del soberano y tenemos

usted lo va a poder comprobar seguramente en breve los valores los mercados nos reconocen

las hipótesis tenidas en cuenta para la elaboración de este escenario incluidos los precios del petróleo señor gordillo

una recuperación fuerte del entorno de la comunidad vasca si bien las tasas interanuales

serán todavía negativas en el primer trimestre de este año eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna gordillo jauna zurea da hitza

no me da usted satisfacción ni a mis preguntas ni a mis preocupaciones

no los han dado usted ha citado datos generales claro es que está citando datos generales acaba de revisar a la baja al seis coma siete por ciento al seis coma siete por ciento le llevo diciendo desde finales del año pasado que el ocho coma nueve me parecía excesivo bueno me da la razón

y el hispalink que ha citado usted es que da una previsión de crecimiento del cinco por ciento

intentar edulcorar una cosa una noticia una mala noticia y una que es tremenda lo está intentando edulcorar y lo que está intentando hacer es irnos poco a poco bajando la tasa de crecimiento hasta que lleguemos a la que es la real

mire señor consejero todavía no me ha dicho

a los terribles a los retos que tenemos que son muy graves y que sobre todo son muy importantes

y hemos presentado un montón de enmiendas tendentes sobre todo a realizar

la deuda no debe estar para pagar el gasto corriente esto usted lo sabe esto usted lo sabe la deuda está

implícitamente lo que está queriendo reconocer es que en breve vendrá a decirnos que volvamos a pedir un poquito más de deuda porque no le llega es que tiene toda la pinta señor azpiazu mire nosotros le pedimos al gobierno en una situación así lo normal para empezar lo normal sería que usted estuviera aquí al lado del lehendakari

es que es muy importante su labor y la de su departamento la de su consejería es importantísima es que es ahora mismo la más importante nosotros ahí lo que tendríamos que tener es una reunión tendría usted que tener una reunión semanal con todos los portavoces de economía

porque claro lo que no puede hacer es tener un gobierno de coalición con una mayoría absoluta que traen aquí como un rodillo y luego le piden a la oposición hala adhesión

si presentas enmiendas oiga es que encima resulta que somos desleales mire

nosotros le insisto en lo que le ha dicho esta mañana el señor iturgaiz al señor urkullu

y devolverlas al sector productivo para que mejore la actividad económica hay que mejorar la estrategia de vacunación eso no es de su departamento pero es que es importantísimo

usted sabe que en economía esto lo explico yo incluso en las clases de derecho constitucional la seguridad jurídica es fundamental es absolutamente fundamental

para que la economía pueda funcionar es absolutamente fundamental y lo que no es de recibo es que un día el gobierno nos llame y nos diga que bueno que está pensando que a lo mejor hace una ley antipandemia que no se sabe que en fin que no tiene nada escrito que tal

ante un público que ya está un poquito cansado y a veces parece que incluso aburrido se hace una rueda de prensa para presentar una proposición de ley antipandemia para saltarse para saltarse los mecanismos parlamentarios y la seguridad y el procedimiento que establece la constitución el estatuto y nuestro reglamento

la cojua para saltarse todos los informes preceptivos y para sacar del debate público y trasladar al parlamento la responsabilidad por qué quieren hacer una ley de estas antipandemia le intentan poner un nombre que sea atractivo

lo que pretenden es saltarse a la torera saltarse absolutamente a la torera

un fraude en toda regla es un fraude en toda regla que va a quedar disfrazado con la mayoría absoluta que ustedes tienen pero va a seguir siendo un fraude es una ley con muchas aristas porque va a afectar a derechos fundamentales y cuando se afecta al contenido esencial de los derechos fundamentales hay que recurrir a leyes orgánicas y además de todo eso hay que tener muchísimo cuidado esta es la ley no es la ley de la pataleta como dijo en su día

y esto sí que se lo han debido asesorar bien le han dicho que claro que sí aprobamos una ley los jueces del

pero claro esta ley de la venganza como ya se sabe acabará en el tribunal constitucional y será malo para todos porque habrá que volver otra vez al principio

y de cuentas públicas mire usted dice que la buena cifra de previsión es del cinco por ciento si alguien le dice que va a ser el cuatro le va a parecer esa la buena con lo cual

previsiones en mejores condiciones para la economía vasca que otros bien le dije que íbamos a revisar las cifras hace una semana y efectivamente aquí estamos revisando estas cifras mire yo le parafrasearía a keynes al dirigirse a hayek en una de

y en la que le dijo oiga mire mire yo cuando las circunstancias cambian cambio y usted

yo creo que la realidad es para analizarla para seguirla y para luego adaptar las previsiones a

ningún problema pero cuando damos el dato que damos es por lo que entendemos que debemos dar en ese momento con la información que tenemos ese dato no estamos manipulando los datos estamos analizando

del contexto en el que nos encontramos nuestras cuentas presentaban antes de esta pandemia una solidez envidiable con el

diecisiete y la pandemia nos cogió afortunadamente con unas cuentas saneadas que han sido capaces de responder a las tensiones generadas este último año

con un aumento de más de setecientos millónes de euros

con una inversión de novecientos cincuenta y cinco millónes de euros que suponía un aumento

un aumento del nueve coma siete por ciento esos son hechos son datos son políticas son actuaciones precisamente para salir de esta situación he señalado en multitud de ocasiones

al máximo de su capacidad de endeudamiento para hacer frente a unos años clave para la recuperación económica de hecho próximamente vamos a salir al mercado con una emisión de bonos sostenibles por valor de mil millónes de euros que permitirá al gobierno a reforzar su sólida situación financiera

de más recursos de cara a futuro afortunadamente la recaudación el año dos mil veinte no ha caído tanto como inicialmente teníamos previsto aunque algunos parece que hubieran preferido

a una decisión voluntaria del gobierno para reforzar la capacidad de actuación endeudándonos por encima de lo estrictamente necesario para cubrir el déficit queríamos tener

por si hay que actuar de una forma más contundente porque lo hemos dicho no vamos a

contempladas en las zonas de actuación preferente por ciento ochenta millónes de euros le digo más

se cerrará en torno al uno coma uno por ciento junto a esto vamos a gestionar cerca de doscientos cuarenta millónes para poder dar ayudas directas a los sectores más afectados

para hacerlo lo antes posible la ley de presupuestos contempla la adicionalidad de los fondos europeos

y cuando lleguen seremos capaces de gestionarlos con eficiencia ya que tenemos diseñado nuestro propio plan euskadi next tenemos identificados los ámbitos estratégicos de este país

económico y social nuestra ruta está bien marcada y con la mirada puesta en la transformación y en la reconstrucción económica

para seguir transitando el camino hacia la reconstrucción y la recuperación

los retos de la transición energético ecológica y la digitalización que son claves de futuro

no prevemos un periodo de recesión para la economía vasca aunque podría darse

la ralentización a la que se refiere en su pregunta se producirá en mayor o menor medida en función de nuevas cepas del virus usted también lo ha apuntado

son una clave para conseguir una recuperación rápida de la economía de este año y el próximo confiamos

al cumplirse un año de la llegada de la pandemia eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna gai zerrendako

en euskadi tenemos un problema consistente en que miles de familias vascas no pueden escolarizar a sus hijos en la lengua mayoritaria de todos los vascos y digo no pueden

la prensa publicó una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo de vitoria gasteiz que no es nada más que un síntoma de este gravísimo problema que en algún momento habrá que abordar y habrá que corregir según dicha sentencia se condena

como única forma de poder estudiar en el modelo a y

de qué opina usted de esta sentencia cómo la valora

qué medidas va a adoptar o ha adoptado ya para asegurar que ese derecho se va a cumplir y que cualquier vasca que quiera educar a su hijo en el modelo a pueda hacerlo qué medidas va a adoptar usted para que esto no vuelva a ocurrir nunca más con ningún niño en euskadi gracias

se enmarca dentro de la interpretación de la literalidad de los requisitos para tener derecho a una beca en la orden de diciembre del dieciocho por la que se convocaron las asignaciones individualizadas de transporte escolar y no

y los modelos educativos el marco de referencia básico de esta orden

y en su artículo quinto se regulaban los requisitos del derecho al mismo la administración educativa interpretó que no se daban las condiciones o no se cumplía dicho artículo

el departamento ya ha dado los pasos para ejecutar la sentencia proceder a estimar el recurso contencioso administrativo y efectuar el pago a la mayor brevedad

se publicó el decreto ciento ochenta y seis barra dos mil diecinueve de modificación del decreto de transporte escolar este decreto modificó el artículo objeto de discrepancia
de una manera más precisa el objetivo es precisamente evitar estas interpretaciones distintas por las partes eskerrik asko

gil jauna zurea da hitza entiendo señor consejero que usted quiera limitar

simplemente a un tema de transporte o a un tema de becas pero la realidad es que el problema

nada más que poner encima de la mesa una problemática que llevan años sufriendo muchas familias vascas y por la que ya me dirigí a usted en el pleno de control del día diecinueve de febrero

ese día usted terminó esta intervención diciéndome no le parece que tenemos ya suficientes problemas como para buscarlos donde no los hay esta pregunta creo que hoy se responde sola porque queda de manifiesto queda en evidencia esa maniobra no es que no haya el problema es que usted no quiere verlo porque no interesa

que un alto porcentaje de las familias vascas tienen para algo tan elemental como que sus hijos puedan estudiar

en ese sentido usted le recuerdo es el consejero de todos los vascos no solamente de los nacionalistas no solamente de los euskaldunes de todos los vascos y debería estar

y mire la sentencia lo dice muy claro se evidencia el absoluto cinismo

de la administración pública y se refiere a su departamento en concreto y por ende el artículo

habida cuenta de la discriminación del niño en el acceso a asignaciones para el transporte escolar y como consecuencia de la elección de sus progenitores del modelo educativo a

pretendido por los padres por no ser posible ni viable la conformación de un grupo que ese fue su argumento y es un argumento que llevan repitiendo mucho tiempo

beneficios en un área que incide directamente sobre un derecho fundamental como es el derecho a la educación artículo veintisiete de la constitución

en la lengua de todos los vascos entonces señor consejero le vuelvo a instar a que tome las medidas para garantizar ese derecho y en consecuencia ponga en marcha el modelo a
en todos los colegios públicos de euskadi en el próximo curso gracias eskerrik asko gil jauna bildarratz jauna zurea da hitza

este caso es puntual y hace referencia exclusivamente a la concesión de una beca de transporte escolar es más en este caso en concreto se garantizó la voluntad de la familia a la hora de elegir el modelo educativo incluso fuera del periodo de escolarización ordinaria

y así lo hizo este no es un tema de modelos el departamento realizó las gestiones para

y como ya le indiqué en el pasado diecinueve de febrero este es un derecho que asiste a las familias y es un derecho que las familias ejercen de manera consciente y responsable

para sus hijos e hijas y puedo avanzarle con los datos provisionales de matriculación que el modelo a ha sido elegido por el tres coma ocho por ciento de las familias

y como ya le trasladé recientemente insisto en proponerle un cambio de actitud insisto en proponerle la conveniencia de adaptar su discurso a la voluntad libre y real de las familias vascas en lugar de seguir tratando de hacer ver

desde hace veintiocho años e insisto también en subrayar

que todas las evidencias pedagógicas y profesionales recomiendan estos modelos educativos las familias los eligen y las instituciones los avalan este parlamento los apoya de forma mayoritaria cuasi completa

nuestra sociedad y su realidad sociolingüística eskerrik asko

es un derecho básico pero esto es solamente un cuento un cuento más en el país de nunca jamás pero consejero nosotras las jóvenes no somos como peter pan y vamos creciendo y madurando

buruhausteak ematen direlako eta disgustuak ugariak direlako y vemos clarísimamente que las políticas de vivienda planteadas por este gobierno pues no son suficientes si lo fueran todas nosotras tendríamos una vivienda y estaríamos emancipadas en cambio

un bodrio un verdadero bodrio y tenemos que negociar con nuestras caseras y nuestros caseros hasta el último euro del alquiler porque tienen manga ancha para poder hacer lo que les da la real gana eta gu ezin gara batzuen interes partikular

hace escasamente un mes comparecí en esta cámara para responder a una pregunta realizada por usted sobre la idoneidad y los resultados del programa gaztelagun

cambio en la formulación me interpela sobre las dificultades de la juventud para acceder a una vivienda asequible este

me ocupa y me preocupa y al que estamos dedicando una atención importante

la edad media de emancipación de las personas jóvenes en euskadi

en los treinta años siendo de las más altas de europa mientras

es de veinticuatro años lo que significa que los jóvenes se emancipan de media seis años más tarde de lo que les gustaría es evidente

entre los que se encuentran la carestía del acceso a la vivienda y la escasez de la oferta

la precariedad e inestabilidad laboral y los altos niveles de desempleo las soluciones deben trabajarse pues

que al igual que nosotros tanto el departamento de trabajo y empleo en el ámbito laboral como el de igualdad justicia y políticas sociales con el proyecto de ley vasca de juventud

el acceso a una vivienda asequible es una de las cuestiones más demandadas por nuestra sociedad

y sus consecuencias económicas y sociales no van a hacer sino acrecentar esta necesidad sobre todo en las capas sociales más desfavorecidas entre ellas

está centrada en articular políticas sostenidas en el tiempo que nos permitan seguir avanzando para poder disponer de un parque público de vivienda protegida potente pero vayamos por partes usted se interesa por las medidas que vamos a adoptar para favorecer el acceso a la vivienda de las personas jóvenes y permítame

que le cuente lo que ya estamos haciendo porque siendo conscientes del problema ya hemos desarrollado una batería de medidas específicas dirigidas precisamente a favorecer el acceso de la juventud a una vivienda la primera de las medidas que ha puesto en marcha nuestro departamento la ha citado usted

este programa nació en dos mil diecinueve con la intención de apoyar la emancipación juvenil a través de prestaciones económicas para el pago del alquiler no fue una propuesta desarrollada a instancias de ningún grupo social o político sino una iniciativa surgida

porque entendimos que buena parte de la juventud quedaba en muchas ocasiones de hecho fuera del acceso al sistema social de alquiler por tener trabajo y superar

de ingresos mínimo o no tener cargas familiares dar una alternativa a esta situación

autónomo con unas prestaciones específicas durante tres años consecutivos fue el origen de gaztelagun en apenas dos años ha ayudado

que además cuentan con otras herramientas para acceder a una vivienda

como usted sabe y he explicado en más de una ocasión en este foro nuestro departamento se distingue por realizar procesos de evaluación permanentes de los programas en marcha

y como consecuencia de ello ajustó sus requisitos en su primer año de vida mejorando sustancialmente sus resultados en una coyuntura

en un ciento veintisiete por ciento las personas beneficiarias durante dos mil veinte

por otra parte puedo anunciarle que en breve vamos a aprobar una orden de medidas financieras

va a incrementar el precio máximo de las rentas de las viviendas en todos sus tramos alcanzando los setecientos setenta y cinco euros en las tres capitales bilbao donostia san sebastián y vitoria gasteiz los setecientos cincuenta en las áreas metropolitanas

y los seiscientos setenta y cinco en el resto de municipios

lo comento aquí porque sé que a usted le preocupan las rentas máximas de las viviendas admitidas en el programa gaztelagun

a la estadística del mercado de alquiler una herramienta que nos proporciona los precios reales de los contratos de arrendamiento vigentes en cada municipio

unas medias de los contratos de ochocientos ochenta euros en donostia san sebastián setecientos cuarenta y dos en bilbao y seiscientos doce en vitoria gasteiz

evidentemente hay zonas que están por encima de estas medias y otras que se sitúan por debajo esto pasa en todas partes también en donostia san sebastián

que a propósito usted me decía que no había viviendas que pudieran acceder al programa gaztelagun y hemos

más de doscientos ayudas en donostia san sebastián precisamente

como bien conoce la cuantía máxima coincide con la destinada a la prestación complementaria de vivienda

doscientos cincuenta euros mensuales es decir guarda una coherencia con el resto de ayudas dependientes del gobierno vasco destinadas al pago del alquiler de vivienda y parece lógico que sea así que

pero no superior a las recibidas por las personas con el derecho subjetivo a la vivienda reconocido otra cosa es el requisito de ingresos máximos para acceder a estas ayudas y aquí la discriminación positiva a favor

es meridiana meridiana hasta tal punto que para acceder al derecho subjetivo los ingresos máximos por un miembro

con dos miembros derecho subjetivo doce mil gaztelagun veinticuatro mil el doble con tres o más miembros

el doble la segunda medida que estamos impulsando es la construcción de alojamientos dotacionales una fórmula especialmente pensada para favorecer la emancipación juvenil

y por su carácter rotatorio ya que permite un alquiler máximo de cinco años el propósito es que los jóvenes puedan iniciar allí su proyecto de vida autónoma y puedan encontrar en este tiempo otra vivienda más estable para vivir ya sea en propiedad ya sea en alquiler de forma que el

puedan ocuparlo otras personas jóvenes que se encuentran en una situación similar

a ese mismo alojamiento en euskadi

con mil seiscientos veintidós alojamientos una parte ya en uso seiscientos veintiocho

o proyecto pero para poder seguir avanzando en esta línea de trabajo necesitamos la implicación de los ayuntamientos y su colaboración especialmente

de suelo municipal la tercera de las medidas que hemos desarrollado es de carácter general pero afecta directamente al colectivo juvenil

desde dos mil diecinueve los y las jóvenes tiene reservado un cupo preferente de hasta el cuarenta por ciento

y segundas adjudicaciones del parque de alquiler del gobierno vasco cupos que se determinan en la orden de inicio de los procesos de adjudicación teniendo en cuenta el porcentaje de cada colectivo que representa sobre el total de las personas o unidades convivenciales inscritas en el registro de solicitantes de vivienda del municipio

como ve la juventud es uno de los colectivos en los que estamos centrando e intensificando nuestras acciones porque somos conscientes de las dificultades añadidas que tienen para poder emanciparse pero como ya he apuntado al comienzo de mi intervención este tipo de iniciativas se deben de incardinar en un marco

distintas actuaciones la promoción de nueva edificación y la captación de vivienda vacía un sistema amplio de prestaciones económicas

y penalicen lo contrario llegando incluso a medidas como el alquiler forzoso la expropiación y en última instancia la expropiación de las viviendas que no cumplan con su función social
reiterada todo ello actuando sobre la oferta y la demanda con políticas serias coherentes y sostenibles eskerrik asko arriola jauna

entiendo la coherencia que están llevando en las políticas de vivienda lo entiendo todo entiendo también los datos ya me los he estudiado un poco y puedo entender

en qué caminos vais también me sé las características de gaztelagun y creo que

lo de las viviendas dotacionales puede llegar a ser una buena opción pero sabemos perfectamente que en estos momentos y como lo decía antes si la precariedad es tan amplia y seguimos siendo precarios cuando tenemos incluso treinta y pico años

de tu vida concreto en esas viviendas luego también necesitamos otras políticas concretas o otros planteamientos de vivienda concretas para poder emanciparnos en ese sentido

eta gazteen ezinegonari hauspoa eman diozuenak y hoy nos traigo una pancarta para que luego no digáis nada sobre mí hoy vengo con un gráfico serio como una buena señora parlamentaria como todas vosotras

pero lo que no puede negar es que los jóvenes son un colectivo de atención preferente para este gobierno en materia de vivienda

gaztelagun es un programa pionero una ayuda que además proporciona estabilidad

no hay en españa ninguna prestación de esas características que ofrezca a los jóvenes la posibilidad de complementar el pago de su alquiler durante tres años consecutivos no hay hay otros programas

con presupuestos limitados que no llegan a todos los que cumplen las condiciones teóricas para acceder a estas ayudas nosotros tenemos una convocatoria abierta

para que ningún joven tenga que competir con otro porque en nuestra opinión eso no sería una ayuda sería más bien una lotería además

un efecto multiplicador en euskadi desde su puesta en marcha casi una veintena de municipios vascos han desarrollado sus propias ayudas a la emancipación juvenil y todas casualmente con la misma cuantía máxima

que aparecen en gaztelagun usted siempre hace referencia a que las rentas máximas

que en breve las vamos a incrementar y que además al margen de que haya que ajustarlas y lo vamos a hacer

como le he comentado el propio informe juventud emancipación y necesidades de vivienda en euskadi dos mil diecinueve al que

cuatrocientos cincuenta y uno euros y los setecientos cincuenta euros mensuales

pero todos sabemos que el problema fundamental no es tanto que haya más o menos vivienda de alquiler a ese precio que lo es el verdadero problema es que en euskadi

tan solo el trece coma tres por ciento del total de las viviendas principales la pregunta es qué podemos hacer para incrementar esta oferta

para que sean efectivas a las políticas de vivienda tienen que ser integrales

amplio hay que actuar simultáneamente sobre la oferta y la demanda de vivienda y conjugar medidas de promoción y estímulo con otras restrictivas

de la nueva edificación y de la captación de vivienda vacía en euskadi disponemos ya de un parque público de casi veintiséis mil viviendas de las cuales son gestionadas por el propio gobierno vasco para finales de dos mil veintiuno queríamos alcanzar las siete mil doscientos viviendas captadas a través de bizigune a ello

prevista para mediados de este año que prevé la penalización de las viviendas vacías con un canon económico además disponemos de un sistema de prestaciones económicas de vivienda para el pago del alquiler de las que se benefician todos los meses más de treinta mil familias

y queremos que esas prestaciones al alquiler se actualicen en el año veintidós elevaremos también a la categoría de programa estructural

temporal de tres años a partir de dos mil veintidós será una línea subvencional permanente vinculada coherentemente al conjunto de prestaciones al alquiler y hemos propuesto una reforma fiscal que plantea modificaciones en el irpf para las rentas que se sitúen por debajo de las fijadas

y penalizaciones para quienes la sobrepasen y en el caso de los arrendatarios intensificar las deducciones para diversos colectivos

numerosas euskadi cuenta con una cobertura social en materia de vivienda que no tiene parangón en el resto de españa nos queda mucho camino por recorrer sí pero créame

ni golpes de efecto sin esfuerzo mantenido y trabajo coherente muchas gracias eskerrik asko

muchas gracias presidenta buenos días de nuevo a todos a consejeros señorías bien señor arriola

malas noticias qué pasa con el tren de alta velocidad sería nuestra pregunta usted es del partido socialista de euskadi y del partido

donde el pnv es socio preferente del señor sánchez del señor

y sin embargo estamos viendo un lamentable momento de parálisis en relación con nuestra principal

como desesperante retraso del tav la alta velocidad señor arriola

recuperación económica que deberá venir tras la pandemia nos encontramos con importantes

que ya la llevan desarrollando lo están desarrollando y la desarrollarán mucho antes que nosotros y el ministerio de transportes parece que se dedica a hacer además aún

en ese sentido a qué incumplimientos responde esta situación usted ha dicho

de dos mil veintiséis o principios del veintisiete es decir con tres años de retraso

es decir importante retraso importantes incumplimientos señor
arriola cuáles son las razones de verdad del aplazamiento de dos mil veintisiete de la llegada a euskadi del tren de alta velocidad muchas gracias eskerrik asko

barrio jauna arriola jauna zurea da hitza gracias señora presidenta como usted

el ministerio de transportes sitúa en el horizonte de dos mil veintiséis veintisiete

de las ciudades de bilbao a vitoria gasteiz que están actualmente en fase de estudio informativo y tramitación de informes ambientales como usted conoce

y ha tenido que superar desde sus inicios muchos momentos y situaciones especialmente difíciles entre ellas le recuerdo

y una profunda crisis económica además la tramitación de los estudios informativos y las autorizaciones ambientales de todo tipo y competencia administrativa

han contribuido también a alargar los tiempos de ejecución a día de hoy teniendo en cuenta el estado de la situación de cada uno de los tramos de las obras en marcha y de las actuaciones pendientes

más allá de los deseos es una estimación realista eskerrik asko arriola jauna barrio jauna

gracias presidenta gracias señor arriola bien precisamente eso la amenaza de eta que bien conocemos

servir una vez derrotada la banda de acicate para su finalización eso está bien claro y haber puesto todos los esfuerzos que se

también es complejo esas infraestructuras en otras partes de españa y se están haciendo y del mundo y se hacen y se han acabado y se han empezado mucho antes su planificación

por qué es tanto incumplimiento porque forma parte de los incumplimientos de la administración allá en junio de dos mil diecisiete se presentó el cronograma en dos mil dieciocho había una declaración de impacto ambiental positiva en dos mil diecinueve

había un gobierno que lo defendía pero bueno todo cambió en dos mil dieciocho y el único paso que se ha dado es hacer público el primer estudio informativo es decir todo es incumplimiento todo es lentitud todo es retraso y en otros sitios no en otros sitios

aún no se han respondido no además eso el consejero duda de la necesidad del soterramiento

necesidad del soterramiento seguramente a ver si se va a hacer sin fecha

sin sociedad de integración en bilbao y la alta velocidad desarrollándose en

por estas fechas que se inauguró el ave madrid sevilla hace treinta años y así estamos son malas noticias las que nos da señora arriola parece que falta convicción muchas gracias

gracias señora presidenta cada uno es heredero de lo que es y efectivamente

y vemos cuándo se ha actuado cuándo se ha invertido y cuándo se ha dejado de invertir y cuando se ha bajado estrepitosamente la inversión precisamente es en los años de gobierno popular o sea señor carmelo barrio

de nada de nada porque esto es evidente y está

de cualquiera que quiera verlo la situación que tenemos a día de hoy es que en el ramal guipuzcoano que está desarrollando nuestro departamento están terminados

y los correspondientes al apeadero de astigarraga y las estaciones de ezkio y de atotxa

que ejecuta directamente adif se sigue avanzando once de los diecinueve tramos ya están finalizados siete se encuentran

de un proyecto modificado la previsión es que la plataforma ferroviaria

y que a continuación se avance en las instalaciones vías electrificación de trazado sistema de seguridad etcétera

se encuentran en los accesos y estaciones de vitoria gasteiz y bilbao y sus respectivas integraciones urbanas

nuestra intención es poder participar en la ejecución mediante encomiendas de gestión en los tramos de acceso a ambas capitales

he mantenido un contacto continuo con el ministerio y fruto de estas conversaciones es el impulso

en bilbao en ella hemos acordado establecer un grupo de trabajo

y nos hemos emplazado para junio con el objetivo de seguir dando nuevos pasos

espero también que el ministerio convoque en breve plazo la sociedad para la integración ferroviaria de vitoria gasteiz

pero repróchese a usted mismo al gobierno del partido popular porque si la situación que tenemos es la que es viene derivada fundamentalmente de la falta de inversión de la bajada estrepitosa de la inversión entre los años trece y año dieciocho inversión que se está recuperando a partir del dieciocho como ha podido usted observar

nos toca trabajar y seguiremos trabajando no tenga ninguna duda con toda la responsabilidad eskerrik asko arriola jauna